legebiltzarkideok euskal kooperatiben mugimenduaren ordezkariak egun on guztioi es una gran satisfacción para mí poder presentar ante el pleno de esta cámara

hace un año exactamente el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho el consejo de gobierno aprobaba el proyecto de ley sobre el que ustedes han debatido y cuyo dictamen es objeto de este primer punto del orden del día por parte del departamento de trabajo y justicia se cumplió el programa legislativo y ustedes señorías han realizado un arduo trabajo de análisis y debate sobre el proyecto a lo largo de este ejercicio

fue consecuencia del interés que mostraron los firmantes del acuerdo de gobierno por el movimiento cooperativo vasco y la importancia del mismo en nuestra realidad económica y social

etorkizuneko erronkei aurre egiteko no me voy a extender en la explicación del proyecto de ley pues es a sus señorías a quienes corresponde hoy el debate en profundidad sobre el mismo

del contenido y del proceso seguido para su elaboración el movimiento cooperativo vasco representa un sector dinámico y fundamental de nuestra economía social y de la economía vasca en general

y además son empleos de calidad partiendo del principio de que las leyes han de ser instrumentos útiles para la ciudadanía nuestra primera apuesta fue la de implicar al sector el proyecto con su colaboración si lo que se pretende es que las cooperativas vascas cuenten con una herramienta que facilite su trabajo el objetivo ha de ser

los receptores de las medidas contenidas en el proyecto de ley gure solaskide nagusia euskadiko kooperatiben goren kontseilua izan da sektorea ordezkatzen duen erakunde organo baita eta hasieratik aritu gara lanean confecop eta erkiderekin pero también debido a que la ley abarca tanto aspectos generales como más sectoriales se mantuvieron contactos y se ha contado con las aportaciones del grupo mondragón de la federación de cooperativas de vivienda bizikoop de la red de economía alternativa y solidaria y

también quiero resaltar la cooperación de las tres universidades vascas quiero agradecer a todas estas instituciones y a las personas que las han representado su colaboración

alcanzado del que el departamento de trabajo y justicia nos sentimos especialmente orgullosos no quiero olvidar en este apartado de agradecimientos el buen trabajo realizado y el empeño por superar las dificultades mostrado por las personas que integran la dirección de economía social junto con asesores del departamento y con jokin díez el director de economía social a la cabeza esto en cuanto al proceso seguido para la elaboración del proyecto de ley

van dirigidos a consolidar y reforzar el movimiento cooperativo vasco sin perder ninguno de los aspectos característicos y valores del cooperativismo hemos querido dotar al sector de un instrumento útil para compaginar el carácter social avanzado de las cooperativas con el reto de competir en un mercado global

y sujeto a constantes incertidumbres entre los objetivos más concretos sin ser demasiado exhaustiva pues ustedes profundizarán en ellos quisiera destacar nuestra voluntad de refundir

en un solo texto normativo las modificaciones legales surgidas en los últimos años clarificar la responsabilidad de los socios en el supuesto de que se generen deudas sociales

e incorporar otros tipos como son las de fomento empresarial o las junior cooperativas

para reforzar su consideración de interés social regular diferentes cuestiones del gobierno corporativo adoptándolo a la evolución de su normativa dotar de flexibilidad

que puedan ser modificados por la vía estatutaria o del reglamento de régimen interno

en el articulado del proyecto señorías como les decía es un breve resumen de lo que aspiramos a conseguir si ustedes aprueban el proyecto y acaban convirtiéndolo en

ha sido un trabajo diligente con un resultado enriquecedor que se puede apreciar sin duda en el dictamen sobre el que hoy van a decidir por resaltar las aportaciones más relevantes incorporadas en la tramitación parlamentaria voy a referirme a la integración en este texto de la ley

el refuerzo del carácter de género del proyecto que ha sido complementado con la obligación de establecer medios específicos

la incorporación en el consejo superior de cooperativas de euskadi de representantes de las diputaciones forales

otras medidas que fomenten y difundan los valores del cooperativismo y permitan la creación de proyectos cooperativos en procesos de crisis empresarial en conclusión

consensuado con el sector que responde a los retos de nuestro movimiento cooperativo que sin duda reforzará el modelo y la referencia internacional de euskadi en este ámbito que apuntala

y con el empleo de calidad estoy segura que ustedes no van a perder la oportunidad que se nos crea con la aprobación de este proyecto y su conversión en ley besterik ez eskerrik asko

lehendakari consejeros consejeras señorías representantes del movimiento cooperativo del mundo cooperativo buenos días a todos y a todas es un día importante desde luego para esta causa que compartimos muchos la aprobación de esta ley además estamos dando

un instrumento una herramienta y ahora se puede exigir desde luego que la aprovechen para la creación de empleo

para aumentar la investigación los avances tecnológicos y la internacionalización es un buen instrumento para todas esas cuestiones que tanto necesita el país tienen

con las características de esta ley y sus oportunidades de contratación y su flexibilización empresarial

que mira a la moderna sociedad cooperativa que mira a los socios que supera algunas obsolescencias y que refuerza la autonomía de regulación adaptada a cada proyecto cooperativo y estos recursos las cooperativas y sus estructuras asociativas los tienen que aprovechar ya que también

el mundo cooperativo es una seña de identidad de este país y ello desde nuestro punto de vista en pleno respeto a los principios cooperativos se aprobó en mil novecientos ochenta y dos la ley uno barra

un desarrollo cooperativo yo recuerdo la tramitación y aprobación de la ley cuatro barra mil novecientos noventa y tres de veinticuatro de junio en la que tuve el honor también de ser ponente

como referencia la legislación sobre cooperativas a partir de ese momento en españa siguió este modelo un modelo

han pasado más de veinticinco años y era necesario reformar hacerlo de la mano del sector y mirar a las nuevas realidades nuevas realidades que nos imponía

las necesidades en regularlas las nuevas clases de cooperativas las normas de contabilidad y economía la situación de los socios en la cooperativa es decir nuevas fórmulas de transparencia de gobernabilidad de gestión de una empresa de economía social

este proyecto de ley que hoy aprobaremos se presentó el once de marzo de dos mil diecinueve como ha dicho la consejera el proyecto de ley han sido nueve meses de intenso trabajo y de fructífero trabajo estamos satisfechos y llegamos al trámite final del procedimiento legislativo

una nueva ley vasca de cooperativas desde luego ha tardado porque la legislatura anterior también se presentó pero ha llegado y ya la vamos a aprobar una necesidad sentida por el sector asumida

asumida por las instituciones por los partidos y orientada como se ha dicho a la modernización a la flexibilización a la transparencia a la democracia cooperativa

organización como todos ustedes saben de carácter consultivo de la onu una enmienda de nuestro grupo ha incluido

cooperativos que es necesario recordar porque vendrán después del trámite parlamentario incluidos también era necesario y bueno hay que tener referencia la asociación voluntaria y abierta el control democrático de los miembros la participación económica de los socios la autonomía e independencia la educación formación

el sentimiento de comunidad son valores todos ellos dentro del concepto más amplio que es la economía social que no es un concepto solo teórico sino que en esta tierra tiene toda una realidad constatada en su cuantificación en la excelencia empresarial

indiscutible y esperanzadora utilidad social hemos querido que estas cuestiones

figurasen como relevantes en la exposición de motivos y se ha aceptado

desde otros parlamentos desde otras instituciones y por ello nosotros pues en el debate del proyecto de ley presentamos una serie de enmiendas presentamos treinta y siete enmiendas

y tenemos que decir que fruto del acuerdo y de la negociación en la ponencia se han asumido y transaccionado fundamental de nuestras propuestas son seis las enmiendas que mantenemos para este trámite o sea que treinta y uno tenemos que decir que han formado parte de los acuerdos de la ponencia y desde nuestro punto de vista de lo sustancial de las aportaciones que nosotros queríamos

en algunas cuestiones que son mejoras técnicas o mayor claridad en la ley algunas cuestiones que tienen que ver con la posición del administrador

de reducción de algunos plazos o con la liquidación de cooperativas de vivienda bueno son algunas cuestiones que son más de carácter técnico

su no aceptación de las enmiendas no va a impedir nuestro planteamiento de apoyo a la ley la participación del grupo popular con sus aportaciones creo que ha sido

brevemente aparte de lo que ya he comentado antes que nosotros considerábamos necesario el hecho de que en la exposición de motivos en los fundamentos de lo que el explicativo

desde luego el planteamiento de la economía social su definición y sus modelos legales porque son

este parlamento ha conocido planes hay en marcha planes hemos trabajo monográficamente hay planes de desarrollo de la economía social encargados al gobierno o sea que en ese sentido

dónde estamos y lógicamente en la exposición de motivos también era importante meter el papel de las diputaciones forales dentro del nuevo papel

sí que se ha dicho la consejera también lo ha recordado hemos planteado la integración

de cooperativas de euskadi de la sociedad cooperativa pequeña no entendíamos que la ley seis barra dos mil ocho funcionase al margen o en paralelo

y el texto ha sido el texto unitario y de referencia la sociedad cooperativa pequeña tiene un importante papel se desarrolla y tiene que hacerlo en consonancia en un texto de carácter unitario con lo que es la regulación de las cooperativas yo creo que en ese sentido se profundiza se avanza y se le da seguridad a quien tiene que consultar una ley de referencia tanto si va a constituir una sociedad cooperativa o una sociedad cooperativa pequeña yo creo que ese es un elemento fundamental era lógico

en ese sentido y una cuestión fundamental desde nuestro punto vista también el consejo superior de cooperativas es un órgano importante es un órgano que vigila

el movimiento cooperativo sobre las cooperativas sobre el hecho cooperativo en sí y que tiene atribuidas muchas cuestiones que desde luego nosotros queríamos resaltar había una laguna

del consejo superior de cooperativas y son muy importantes en ese entramado institucional

lo componen las universidades y lo compone el sector pero las diputaciones forales dentro de la concepción además que hay que tener de país tienen un papel relevante en el desarrollo

la fiscalidad de las cooperativas la fiscalidad esencial que son las juntas generales y las diputaciones forales quienes van a canalizar ese esfuerzo de las sociedades cooperativas

hemos conseguido desde luego integrar y se ha asumido desde luego por la ponencia el hecho de que las diputaciones forales sus representantes ahora se establecerá como tienen que estar integradas el reglamento o las cuestiones

desde luego en esa función esencial del consejo superior de cooperativas de euskadi y eso está ahí y después

en la ponencia el hecho de la prevención de delitos en el modelo contenido en estatutos yo creo que se avanza debido al carácter social

se ha establecido en el avance en el compromiso y responsabilidad social de las cooperativas desde luego en los estatutos de cooperativas de más de cincuenta socios establecer en el en los estatutos un modelo de prevención del delito y desde luego un modelo

de avance un elemento esencial vuelvo a decir este proyecto de ley

de que nos están viendo al menos los expertos lo están diciendo así y eso es lo que nos lleva desde luego a apoyar el hecho de que el documento el interesante en un principio apoyado en el sector y con las aportaciones que nosotros

acabo señora presidenta votaremos a favor del proyecto ley y votaremos en contra de las enmiendas de eh bildu y elkarrekin podemos pensamos que estas enmiendas afectarían al funcionamiento de las cooperativas en gran medida afectarían negativamente

dificultarían sus necesidades de flexibilidad de adaptación

instalarían debates políticos que no tienen que resolverse en este momento por las complicaciones

sí que puede haber cuestiones pendientes en relación con la representatividad pero este no será el momento el momento tiene que ser un gran acuerdo un gran pacto que esperemos el gobierno

presidenta es para mí una enorme satisfacción intervenir hoy en este

una nueva ley de cooperativas adaptada a los retos actuales y a los cambios económicos y sociales de los últimos años

a todos ellos la realidad de nuestras cooperativas esta ley va a permitir adaptar a estos cambios esta realidad y afrontar así los retos de futuro que tiene el sector de economía social un sector básico de nuestra economía y de nuestro sistema social hoy traemos a este pleno la aprobación de este informe de dictamen tras el trabajo de enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios dentro de la ponencia constituida

y que ha tenido su última reunión el veinte de noviembre del dos mil diecinueve fuimos pioneros en el estado aprobando una ley de cooperativas en el año

la actualizamos en el año noventa y tres y se hicieron tres modificaciones posteriores en esta nueva ley se refunde e integra en un solo texto normativo varias modificaciones legales en vigor

la regulación de las sociedades cooperativas

y esto nos va a permitir seguir siendo un referente internacional en el desarrollo e implantación de la economía social creo que es importante

muy consensuado lo ha dicho la señora consejera también consensuado con todo el movimiento corporativo donde ha habido una amplia participación también de las universidades vascas y se ha llevado a cabo también por parte de los diferentes grupos parlamentarios un importante trabajo dentro de la ponencia

configurada en el año noventa y tres pero introduce determinados aspectos que adaptan la regulación a las necesidades de la actual realidad social

fórmula cooperativa evitando su instrumentalización interesada o el mal uso de las empresas cooperativas sin que lo sean incorpora aspectos generales fundamentales para nosotros como es

dentro de los diferentes órganos de la cooperativa en un principio en el proyecto de ley se incluía su referencia en la disposición

pero se valoró su inclusión dentro del articulado para dar así mayor énfasis a todo lo referente a la igualdad de género y se acordó introducirlo dentro del artículo

mucho más claro dentro del texto legal que se apuesta por la igualdad de género en los diferentes órganos de la cooperativa revisa la configuración legal

cooperativas y se introducen nuevas como pueden

ofrece una mayor seguridad jurídica respecto de la responsabilidad de los socios en relación con la imputación de pérdidas

tan solo con su aportación de capital sin que tengan que responder con su propio patrimonio clarificando mucho más la situación anterior precisa los deberes y la responsabilidad de los administradores

se puede establecer una retribución pero teniendo en cuenta la dimensión de la cooperativa así como las funciones que los administradores vayan a tener asignadas se busca también la mejora y modernización del consejo

completar en el mismo hasta un treinta por ciento de sus miembros en la búsqueda por una mayor flexibilidad para poder competir con otras empresas se podrá

elevando de un veinticinco que se marcaba en la normativa actual vigente al treinta por ciento el número de horas trabajo a realizar por trabajadores contratados no socios posibilita modificaciones estructurales

que le permitan una mayor agilidad ajustando la normativa cooperativa a las innovaciones introducidas por la normativa sobre

y auditoría de cuentas posibilita la autorregulación

flexibilidad de determinados aspectos en la vía estatutaria o reglamento de régimen interno o en su caso dentro del movimiento cooperativo en el régimen de los liquidadores varía considerablemente respecto de la actual regulación siendo necesario ostentar la condición de persona socia el régimen de cancelación registral se ha flexibilizado asegura el equilibrio entre la operatividad empresarial

uno de los objetivos que se proponen en esta ley es la de modernizar la relación de las cooperativas con la administración pública clarificando la responsabilidad de las cooperativas

bajo parámetros de seguridad jurídica en un mercado globalizado en que las sociedades cooperativas compiten con otras formas jurídicas intenta ser

adecuada entre otras existentes que permita mantener y optar por la fórmula cooperativa como una manera eficaz y diversa de hacer empresa una empresa democrática y solidaria a la par que competitiva hecha por personas y para las personas

se ha enriquecido con múltiples enmiendas que se han introducido y hemos acordado entre los diferentes grupos parlamentarios

una buena ley entre estas modificaciones podemos destacar

se recoge dentro del contenido mínimo de los estatutos cuestiones como la determinación del procedimiento de elaboración y seguimiento del modelo de prevención de delitos así como la incorporación de medios específicos para que la cooperativa sea un ámbito libre

pero se limita para cooperativas de más de cincuenta socios con el fin

situaciones muy gravosas para las cooperativas muy pequeñas incluye que los estatutos podrán prever dentro del consejo rector entre otras cuestiones

se amplía de uno a dos años el plazo para adaptar los estatutos a las modificaciones introducidas en la nueva ley para las cooperativas para dar así una mayor

a todas las cooperativas se introduce dentro del consejo superior de cooperativas de euskadi la presencia en el mismo de las diputaciones forales creo

un gran número de enmiendas que han dado como resultado una ley más enriquecida pero una muy buena ley nos hubiera gustado que esta hubiera sido aprobada por el consenso de todos los grupos parlamentarios creo que no va a ser así si en las votaciones

la misma votación que se hizo al dictamen dentro de la comisión de trabajo y justicia pero considero que es una buena ley que se ha trabajado

por el departamento de trabajo y justicia con el sector cooperativo se han aceptado enmiendas presentadas hemos trabajado bien muy bien dentro de la ponencia mirando enmienda por enmienda técnicamente y siendo aprobadas un número de enmiendas bastante

nos gustaría que siendo una buena ley muy consensuada muy esperada también por el sector pudiera contar con el consenso

parlamentarios no obstante sí que quería agradecer a todos los grupos parlamentarios todo el trabajo realizado para poder llegar

ante esta cámara y que espero que sea aprobado
por unanimidad nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

la modificación de la ley de cooperativas de euskadi que data del año noventa y tres si nuestro grupo tenía dudas al comienzo de este proceso sobre si esta ley sería mejor o peor ahora mismo tenemos una certeza final y es que esta ley va a ser peor que la que teníamos

va a ser peor para el movimiento cooperativo en general y sobre todo para los valores cooperativos aita arizmendiarrietak sustatu zituen baloreak gaur

egon beharko gara hace dos años en un debate sobre el cooperativismo dije que desde el punto de vista económico y social las principales

estabilidad estabilidad en el empleo estabilidad en los salarios y estabilidad en el arraigo de los centros de decisión hoy entre otros gracias por ejemplo al artículo ciento tres que va a aprobar esta ley esa estabilidad sobre todo en el empleo y en los salarios queda más que tocada no solamente se eleva

sino que se establecen una serie de exenciones que son todo un coladero para que en la práctica este porcentaje sea el que cada cooperativa

trabajadores y trabajadoras que estén aportando realizando servicios para la administración como siendo cliente la cooperativa

actúe como empresa de trabajo temporal en aquellos casos en los que existan trabajadores y trabajadoras subrogados

me parece lo más grave en aquellos casos donde exista una negativa explícita de trabajadores y trabajadoras a ser cooperativistas cuando entren a formar parte de la cooperativa es decir se abre de par en par la vía al prestamismo y a las falsas cooperativas que es uno de los objetivos que tenía nuestro grupo cuando

a este proyecto de ley evitar las falsas cooperativas

y es que el reparto de los resultados de la cooperativa establecerán

se les dará un veinticinco por ciento de los resultados que obtengan los socios y socias

así pues con unos salarios bajos y unos resultados altos lo que tendremos

distinto salario y esto no es avanzar

además dije en aquel debate sobre cooperativismo que la principal ventaja que tenían las cooperativas

social no tengo ninguna duda de que esta ley permitirá que esa rentabilidad económica se mantenga pero no así permítanme decirlo la rentabilidad social

el progreso social de un país se basa en reducir la desigualdad tanto la social como la individual y este proyecto de ley que hoy aprobamos no incide en reducir esa desigualdad me llama la atención haber escuchado a la consejera decir que tiene múltiples

avances en cuanto a perspectiva de género cuando nos costó que se admitiera una sola de las recomendaciones del informe de emakunde que se habían hecho hasta setenta enmiendas terminológicas tuvimos que cambiar

ni siquiera se ha admitido el papel que tienen las cooperativas como el resto de empresas en la conciliación de la vida laboral y familiar y ha costado enormemente que se admita la consideración de que las cooperativas sean un ámbito libre de delitos sexuales y de violencias machistas aunque al final tengo que reconocer que lo hemos conseguido no solamente no se han tenido en cuenta

que en el caso de los trabajadores y trabajadoras con diversidad funcional a los que por cierto el proyecto de ley mencionaba como deficientes físicos

no van a contar entre la cuenta de trabajadores por cuenta ajena por lo cual en la práctica nunca van a poder acceder posiblemente a la condición de socios y socias y eso

que se ponga en cuestión la inserción social de este colectivo en términos de igualdad lege berriak

mirar hoy para otro lado hubiera sido más fácil seguir la corriente hubiera sido

de desigualdad y en el potencial de discriminación que contiene esta ley en su articulado admitimos que es necesario consolidar nuestras cooperativas admitimos que estamos en un entorno global incierto y cambiante no solo en lo económico y financiero también en lo social y lo ambiental y admitimos que lo que piden las grandes cooperativas es más flexibilidad y más competitividad trabajar en los mercados globalizados capitalistas pero tengo que decir que en una cooperativa cuando la desigualdad y la precariedad entran por la puerta

a día de hoy las cooperativas con esta ley no tienen más futuro

se establecen en términos económicos en términos empresariales no tienen ningún reflejo

no se habla en ningún momento de excelencia de calidad de valor añadido de innovación de sostenibilidad ambiental de gestión del conocimiento y ni siquiera del modelo

que el propio movimiento cooperativista ha estado proponiendo en los últimos años esta ley la única clave de futuro que establece es tener un colchón es tener una masa laboral con menos derechos y menos salario para que en tiempos de crisis podamos soltar ese lastre y que no

aunque por el camino se puedan ahogar algunos pero con ello tengo que decirlo aquí alto y claro se está ahogando la esencia del cooperativismo que es la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras

o no pero la realidad es que el cooperativismo pese a esta ley seguirá vivo estará vivo

y estará vivo mientras la solidaridad y el deseo de igualdad social sigan en las personas aunque no lo estén en esta ley eskerrik asko

baizik eta biztu eta egokitzea con esta ley

pero incluso para seguir teniendo el desarrollo económico como un medio es preciso competir

pues para materializar la distribución de la riqueza que caracteriza a las cooperativas primero es necesario crear tal riqueza

producir más y mejor es decir aumentar los dos factores básicos productividad y calidad

ni debe perder ninguna de las virtualidades de eficiencia por el hecho de que en la misma los valores humanos disfruten de neta prevalencia sobre los recursos puramente económicos o materiales antes bien

por ello mismo acentuar su eficiencia y calidad puesto que lo social debe acreditarse por lo económico no menos que lo económico debe autentificarse por lo social

opina que por expresarme en estos términos sobre la productividad calidad o la eficiencia estoy utilizando no sé qué visiones neoliberales

un prontuario de una obra más vasta editado en mil novecientos noventa y nueve si no recuerdo mal por el centro otalora

de aretxabaleta donde podrá encontrar las referencias que acabo de mencionar en ese sentido considerándolo como el zénit de la flexibilización de la ley de cooperativas

del veinticinco al treinta por ciento de posibilidad de contratación de trabajadores por cuenta ajena por parte de las cooperativas y si bien es cierto que es un tema en el que hay que guardar una proporcionalidad y un equilibrio esto se da para momentos más excepcionales picos de trabajo proyectos determinados etcétera en nuestra opinión

abre las puertas a la precarización forma parte de un análisis bastante superficial el treinta por ciento

dónde está el límite a partir del cual comenzaría esa precarización en el veintiséis en el veintisiete en el veintiocho por ciento

o dependería de las condiciones de trabajo esas condiciones donde siempre puntuamos a las cooperativas como mejores y ejemplares creemos o no creemos en las cooperativas

a un mismo tiempo hemos escuchado decir a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley que esta medida vale para regularizar una irregularidad que se estaba dando de contratación por encima del veinticinco por ciento permitido permítanme señorías mostrar nuestro desacuerdo sin más adjetivación ni comentario

los las cooperativistas tales como por ejemplo el blindaje de los socios cooperativistas limitando su responsabilidad a sus aportaciones de capital y de igual forma trazando como límite el propio patrimonio en cuanto a la responsabilidad de la cooperativa se refiere

se ofrezca seguridad jurídica ante eventuales casos que pudieran darse

incluida la ley seis barra dos mil ocho de sociedades cooperativas pequeñas al tiempo que se posibilita mediante el fomento de la autorregulación que determinados temas sean cambiados a través de los estatutos y reglamentos

no iba a salir pero el discurso catastrofista del señor becerra me ha preocupado y tengo que decirlo lo que hace el señor becerra y lo que traslada y eso es lo que más me ha preocupado

parte de la crítica es la desconfianza en los cooperativistas la desconfianza en los cooperativistas dese cuenta que son los cooperativistas esas personas quienes decidirán los estatutos la gestión con unas asambleas más reforzadas mayores garantías

es decir dese cuenta que usted desconfía de los cooperativistas o sea de las cuestiones que usted ha hablado

por las personas por los cooperativistas que son los actores desde luego de la acción empresarial de las cooperativas es

socias no lo hará un empresario o un consejero delegado o un gerente los jefes de personal de las cooperativas son los cooperativistas

usted desde luego está equivocado en la dura crítica a este proyecto de ley esa crítica desde luego no la comparte el sector

y yo creo que en el proyecto de ley se han puesto muchos mejores cauces para eso que yo le decía para tener más confianza en el papel de los socios que usted desconfía además de una manera además bastante tajante no se han puesto mejores cauces

anteriormente en el papel de los socios para su ámbito de decisión para su información para cómo incidir en la gestión para la derechos en relación con la transparencia

además siempre desconfían de ámbitos libres de sindicalización agresiva

les gusta sacar el control laboral de los ámbitos de las propias empresas y aquí el control laboral se garantiza en los ámbitos de las propias empresas señor becerra

entendemos que usted desconfíe por su implicación ideológica pero desde luego este proyecto de ley y esta ley hace avanzar a las cooperativas y va a hacer avanzar al país

crecimiento económico y muchas otras cosas a las que ya nos hemos referido porque ahora tienen la obligación las cooperativas de gestionar bien también esta ley

deberes a la administración está bien claro que ha habido cosas que no han funcionado bien en el desarrollo de la ley de mil novecientos noventa y tres en relación con la inspección

cooperativos importantes no que no fueran detectadas y las insuficiencias del pasado pensamos que ahora

que el gobierno también ha tomado interés va a haber más intervención pública debido al carácter y al interés social de las cooperativas no también será importante el papel de este parlamento

tenemos que analizar el desarrollo reglamentario de esta ley pero también tendremos que controlar la acción del gobierno con que esas cuestiones que no han funcionado bien hasta ahora puedan funcionar en relación con las infracciones con la inspección es decir

yo creo que da mucho papel también más papel a la administración que en el pasado

neutralizar actuaciones impropias o al margen de los principios cooperativos que será algo que tenga que analizar la administración juntamente con el consejo superior de cooperativas que ahora tiene un papel
desde luego más reforzado señor becerra usted está equivocado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sí gracias presidenta el grupo socialista está de acuerdo señor barrio también con usted con la preocupación que ha manifestado por el discurso

hoy aquí el señor becerra en representación de elkarrekin podemos estamos acostumbrados últimamente a esos discursos apocalípticos

empeora la ley anterior porque no es cierto usted está justificando algo que es injustificable porque es una buena ley es una ley que ha sido trabajada y tiene un amplio consenso con la representación del mundo cooperativista y además hemos lo hemos enriquecido con numerosas enmiendas que se han introducido dentro de la misma

internacional y usted ha dado aquí en el mundo cooperativo y usted ha dado aquí una imagen que parece que todo está horrendo y que esta situación y que esta ley muchísimo más esa situación y es que no es la realidad de lo que de lo que vivimos sino todo lo contrario es que somos un ejemplo internacional en el ámbito cooperativo y no se abre la vía a falsas cooperativas sino todo lo contrario yo creo que hay medios de control para evitarlas

de economía social con las haciendas con las inspecciones etcétera eso lo ha habido lo va a seguir habiendo y yo creo que se va además a incrementar con esta ley en el futuro y por lo que respecta al ámbito

señor becerra ya he dicho en mi primera intervención que en el texto original se le daba importancia se recogía dentro de la disposición

después a todo el ámbito de la igualdad en el mundo cooperativo

dentro de la ponencia consideramos que a lo mejor era mejor para darle más énfasis todavía que

adicional lo introduciríamos dentro del articulado y se metió dentro del artículo treinta y dos que hace referencia a todos los órganos de las cooperativas para dar

sentido entonces no es cierto que no se le dé importancia sí que se le ha dado y se le ha dado desde el principio luego se le han aprobado muchas enmiendas y usted dice que el gobierno no ha sido valiente en aprobar yo creo que

no se trata de que el gobierno sea valiente o no si sus enmiendas hubieran convencido a todos los grupos de esta cámara

es porque no han convencido a la mayoría de los grupos de esta cámara

dentro de esta ley están puestos los mimbres para el modelo inclusivo participativo con esta ley y con anteriores debates que ya se han llevado a cabo

nosotros no nos hemos doblegado nadie se ha doblegado a lo que quería

dentro de esta ley se recoge la posibilidad de que la representación de las cooperativas pueda estar y puedan formar parte dentro de órganos

de las administraciones pero no creíamos que se tuviera que recoger de una forma específica dentro de esta ley la referencia

sino que esa posibilidad está pero está para todos en general luego en cada uno de esos órganos concretos se tendrá que debatir no tenía que recogerse de una forma específica dentro de la misma

voy a concluir desde luego porque se me acaba el tiempo dando las gracias a los representantes

con nosotros presentes en este pleno por todo el trabajo que han realizado también

de esta ley creo que el resultado de todo este trabajo es que vamos a aprobar aquí

servir para que sigamos siendo referente internacional en el mundo cooperativo y también dar las gracias por todo el trabajo

de toda esta tramitación a los miembros del departamento de trabajo

por todos los grupos parlamentarios de esta cámara para conseguir que esta ley
hoy vea la luz nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

vamos a ver señora sánchez que se haya admitido alguna de nuestras enmiendas no quiere decir no quiere decir que nuestro grupo haya tenido la oportunidad de enriquecer esta ley ni nuestro grupo ni el grupo eh bildu por respeto al buen ambiente que tuvimos obviamente no voy a decir qué enmiendas se admitieron o no

si me gustaría referirme al papel que ha tenido el gobierno en la tramitación de esta ley el gobierno ha sido una mera correa de transmisión ha sido un recadista recadista de una parte de un sector económico ni siquiera un sector económico completo ha sido el recadista de una parte de un sector económico cada vez que teníamos que debatir una enmienda importante

es que esto cuenta con el consenso del sector esto no lo podemos tocar desde cuándo un poder legislativo de un país

desde cuándo desde cuándo ni siquiera se cambió la terminología inclusiva que proponía emakunde ni siquiera eso ni siquiera eso por lo tanto el papel del gobierno desde mi punto de vista y desde nuestro grupo ha sido muy decepcionante porque nuestro grupo sí iba con la intención

de que esta fuera una buena ley la ley que merecía este país

de pronunciarse sus enmiendas ya fueron rechazadas en el anteproyecto solo compareció un colectivo de pequeñas cooperativas invitado por nuestro grupo

y su principal petición que era que las cooperativas de iniciativa social

en las adjudicaciones públicas se dijo que no se dijo que no todas las adjudicaciones públicas todas las empresas cooperativas tendrán la misma prioridad las pequeñas y las falsas sí las falsas

en este proyecto de ley que haga frente a las falsas cooperativas y va a haber falsas cooperativas

este proyecto de ley le permite a las cooperativas gestionar todo tipo de servicios públicos sin límite sin límite y además se establece una gestión mixta es decir puede haber tres o cuatro personas cooperativistas

de la propia administración es la puerta abierta de par en par al clientelismo en este país y esto no es catastrofismo esto lo que hemos dejado escrito en negro sobre blanco en esta ley y además puede haber cooperativas sin cooperativistas

ninguno de sus trabajadores y trabajadoras cuentan como cooperativistas

si soy o no soy catastrofista pero esto es lo que hemos aprobado esto es lo que hemos aprobado entonces entonces esto no es una cuestión de que nuestro grupo o yo mismo tenga confianza o desconfianza en los cooperativistas que creamos o no en las cooperativas como ha dicho el señor urrutia yo

ejerzo como legislador como uno más como ponente y yo aquí solo creo en la ley y en la realidad y la realidad que tenemos ahora mismo

anuncio la empresa araluce cesa la actividad sin previo aviso y deja fuera a ciento cuarenta y uno trabajadores y trabajadoras

esta es la realidad que nos viene qué ha dicho qué ha dicho

qué ha dicho yo aquí me limito a decir que con esta ley que estamos aprobando lo que tenemos es un panorama peor

seguirá queriendo creer queriendo creer en el movimiento cooperativista pero esta ley no refleja los principios

a la que no quería referirme porque durante toda la tramitación de esta ley esto ha sido la gran cortina de humo

y lo tengo que decir así todos los debates todas las comparecencias todas las noticias de prensa han sido sobre

después de vista esta ley cómo no podemos defender que las cooperativas sean empresarios si lo van a ser si lo están siendo ya de primer orden
de primer orden cómo no defender que participen en lanbide pues claro que sí claro que sí eskerrik asko becerra jauna

quería suscribir lo que ha dicho el señor becerra que es cierto que el gobierno ha hablado con ciertos sectores y ha dejado fuera a otros sectores

lo hemos visto en la ponencia y quisiera acreditar que el señor becerra no miente en ese sentido con respecto al señor barrio mira yo le compro cualquier cosa

es que esta ley de cooperativas ha puesto mecanismos para que la administración vigile a las falsas cooperativas y al fraude en general esto no es así y lo he dicho en mi primera intervención euskal herria bildu planteó una enmienda para que se trabajara este tema

no hay ningún interés para que las cooperativas tengan mayor vigilancia y haya mayor persecución hacia el fraude fiscal y hacia el fraude con respecto a las relaciones y creo que es importante y creo que hay que recalcarlo porque usted creo que no me atendió cuando plantee esta enmienda de la manera debida eta aitor urrutia

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor becerra mire yo no entraré

porque realmente creo que

creo que ha aportado ha hecho usted por aportar y ha hecho reflexiones interesantes pero

cuando dice que el problema de base de su argumentación yo también considero que está en la desconfianza hacia el cooperativismo y hacia los cooperativistas

esta ley va a ser peor y yo creo que lo he dicho en mi intervención no conozco todavía

que se haya opuesto a esta ley a la conveniencia y a la necesidad de adecuación de esta ley

que hoy tenemos el honor de tratar

el que los valores cooperativos vayan a retroceder mire mi intervención

así lo he querido hacer y he mencionado incluso la fuente ha estado trufada de frases

por eso les he dado hasta la referencia del libro porque usted decía

salario etcétera pero me reafirman me reafirman en la desconfianza de la que hablaba al principio hay una cosa que han comentado tanto usted como la señora ugarte a mí me produce una profunda desazón que diga que los temas de igualdad han costado porque creo que por parte de este ponente en los temas de igualdad

he hecho reflexiones al respecto desde luego absolutamente favorables a cualquier aspecto relacionado con la igualdad

popular hemos votado a favor de esta proposición de ley de modificación de la ley dos barra dos mil once

a raíz de la orden foral de veintisiete de julio de dos mil catorce cuatrocientos veintitrés del diputado de innovación desarrollo rural y turismo se procedió a la declaración de zona de seguridad para la caza en parte de los territorios municipales de san sebastián y pasaia consecuencia de lo dispuesto en dicha orden foral quedó prohibido el ejercicio de la caza en los puestos fijos pertenecientes a las líneas autorizadas de la línea costera de ulía en los términos municipales de san sebastián y pasaia la federación

dos mil diecisiete se anula parte de la orden de dos mil catorce y se excluye respecto de la zona de seguridad de caza de los términos los principales de san sebastián y pasaia las líneas de puestos fijos de caza

el artículo veintisiete de la propia ley de caza que regula las zonas de seguridad y que dice en su punto dos que en las zonas de seguridad está prohibida la caza con armas

por el órgano competente de la diputación foral que corresponda

antes de la entrada vigor de la ley de caza dado que la zona en cuestión

muy transitada por visitantes por paseantes hay datos de ciento diez mil personas

el tercer lugar más concurrido de la red de conteo de gipuzkoa tras el flysch de zumaia y las campas de urbia en aizkorri esto sin contabilizar

no practican senderismo pero que acuden a las zonas recreativas de estos espacios el ejercicio de la caza en los cuarenta y seis puestos incluidos en el registro veintiuno de la línea ulia mendiola y los veinticinco en la línea mendiola faro de la plata originaría molestias

y del monte en general sin descartar riesgos para la seguridad por la escasa distancia de determinados puestos a los caminos

modificar parte del artículo veintisiete de tal manera que en el punto dos se diga que en las zonas de seguridad está prohibida la caza con armas

a la entrada en vigor de esta ley nos parece que dado los precedentes y la situación singular en este caso

hemos votado a favor de esta propuesta también quiero señalar brevemente que tanto desde alguna diputación foral como desde los propios cazadores

y no es este el momento pero sí quiero dejar constancia de la necesidad de atender estas demandas en la próxima legislatura esto para que vayamos avisados de lo que
deberes que tenemos pendientes nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak

que todavía quedan la ley que hoy aprobamos es una ley

no por ello menos importante se trata de ir adaptando esa ley para darles herramientas a las diputaciones forales que son quienes tienen la competencia

la caza con la conservación de la naturaleza y también con otras actividades que se van haciendo a medida que las poblaciones van modificando sus usos sus costumbres sus hábitos

espacios en la geografía vasca una geografía con mucha densidad de población y pequeña a su vez que

tiene un tránsito múltiple no solo de cazadores sino de

de en fin ciudadanos que se dedican a otras actividades relacionadas con la naturaleza y se trata de darles la mayor seguridad a todos a los que hacen unas actividades y los que hacen otras a medida que el desarrollo humano urbano

de la naturaleza va creando nuevas necesidades hay que ir adaptando las leyes esta ley pretende adaptar eso pretende que la caza se haga

seguridad para los que practican esta actividad seguridad para el resto de la población y para los bienes hay que proteger también desde la acción pública como es este parlamento a la hora de aprobar una ley por lo tanto

que se hace para hacer esta modificación puntual hay unanimidad bueno pues todos de acuerdo estupendo

eskerrik asko presidente andrea bueno no parece nuestro grupo considera que

debe ser compatible con otras actividades que se realizan en la naturaleza pero especialmente cuando estas actividades bueno se realizan en un entorno periurbano o en áreas

intensiva no parece sensato por mucho que lo digan los jueces que la

sobre esas otras actividades que ni dañan el medio ambiente ni a los seres vivos que en él habitan y por lo tanto

apoyar la propuesta que en su momento nos trasladó el grupo nacionalista

tengo que decir que hubiera sido todavía mejor que además de mencionar la potestad de la diputación para modificar estas prerrogativas de la caza

por la seguridad de las personas por la salud pública o incluso por la protección del medio ambiente tal y como establece la directiva cuarenta y tres barra noventa y dos de protección de los hábitats y de la fauna y flora silvestre no ha sido posible pero bueno menos es nada y por lo tanto nuestro grupo agradece la iniciativa de quienes

voy a ser muy breve no me van a poder responsabilizar a mí de retrasar acontecimientos lúdicos después de este pleno y aparte porque este tema

este es un tema que va sencillamente de caza la caza es una actividad legal en este país está practicada por decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos pero

establecer las compatibilidades con otro tipo de usos del territorio normalmente más pacíficos

que son las responsables de la gestión de la caza en un momento determinado decida clausurar unos puestos fijos de caza porque entendía que eran incompatibles con

y con otros usos de ocio ciudadano es legítimo que los cazadores recurriesen a la justicia porque entendían que no era correcto y es justo que el juez en una lectura estricta de la ley de caza vigente mantuviera esos puestos de caza porque la ley decía que los puestos previos a la ley eran inamovibles ahora bien es legítimo justo y lógico

tome la decisión de cambiar la legislación en ese aspecto para permitir a las diputaciones una mayor flexibilidad en la búsqueda de esa necesaria compatibilidad entre las distintas actividades del medio eso es lo que hemos hecho y por eso hemos votado que sí y no me queda más que agradecer a todos los grupos parlamentarios la buenísima disposición que han tenido con esta proposición para agilizar su tramitación y que en el más breve plazo de tiempo posible lo hayamos aprobado eta bukatzeko

para su toma en consideración una proposición de ley para la creación del impuesto sobre estancias turísticas en el país vasco una medida

tasa turística el objetivo que marcamos o que nos marcamos sería establecer una figura impositiva que no tendría un impacto negativo en el turismo

en los servicios públicos y en el propio sector del turismo en nuestra opinión una herramienta mediante la cual las arcas públicas podrían recaudar unos ingresos valiosos para hacer frente a gastos adicionales

y en especial a las ciudades con mayor incidencia del mismo gastos adicionales que sufragan en estos momentos las y los ciudadanos de euskadi y en especial

del turismo gastos como la limpieza viaria la recogida de residuos el tráfico infraestructuras y otros puesto que el turismo sin duda

esta ley no pretende que dichos gastos sean sufragados por quienes nos visitan pero sí busca garantizar su justa contribución para que no sean una carga

de los municipios así mismo sería una fuente de recursos para reinvertir en el propio sector y mejorar el desarrollo equilibrado del mismo en todo el territorio de la comunidad autónoma esta tasa ya implantada como bien saben ustedes en cataluña y baleares así como en alemania

satisfactorios en todos ellos en europa son más los países que tienen establecida una tasa turística que aquellos que no la tienen en el caso de parís por ejemplo este impuesto tiene una larga tradición ya que se aplica desde hace veinticinco años

aplican esta tasa así por poner algunos ejemplos roma desde diciembre de dos mil diez aplica un impuesto de entre tres a cinco euros por noche con posterioridad venecia y florencia en el año dos mil once aprobaron en sus respectivos municipios este tributo

del alojamiento alemania por su parte aplica un tributo a los turistas en los alojamientos que grava con el cinco por ciento del importe de la estancia esta medida la han desarrollado hasta la fecha ciudades como hamburgo colonia o berlín y una tasa similar se aplica también en muchas otras ciudades

que se está generalizando a nivel mundial y en nuestro entorno europeo y que resulta de un gran interés debido a los beneficios económicos que pueda aportar al país de manera especial en el ámbito

en euskadi ha experimentado un aumento importante en los últimos años y eso es bueno de hecho el gasto turístico ha venido incrementándose en millónes de euros lo que representa un incremento

suponiendo un porcentaje cada vez mayor del producto interior bruto del país vasco por lo tanto la evolución creciente de este sector y su impacto en la economía el empleo y en los lugares en los que se concentra son evidentes

requiere de un esfuerzo de las administraciones públicas responsables de la gestión de los servicios públicos y de las infraestructuras necesarias para garantizar un equilibrio entre la atención a la ciudadanía local

que nos visitan y todo ello en nuestra opinión pone de relieve la necesidad de posibilitar la aplicación de este impuesto a las estancias en los establecimientos turísticos del país vasco

sino que quien genera parte del mismo también contribuya con su financiación

distribuidos en tres títulos una disposición adicional una disposición transitoria una disposición derogatoria y tres disposiciones finales el título primero contiene las disposiciones generales hace referencia al objeto de la ley

y regula también la naturaleza la afectación y la compatibilidad del impuesto que se crea con otros tributos

la proposición de ley incluye una disposición adicional que contiene

para que en el plazo de dos años y medio y posteriormente cada tres años elabore un informe de evaluación de impacto de la ley en el marco de los principios generales de eficacia de eficiencia y de sostenibilidad una cuestión que nos parece interesante y finalmente se incluye una disposición transitoria que habilita a las juntas generales de cada territorio

y tres disposiciones finales por las que se habilita a las normas forales de presupuestos a modificar los elementos cuantitativos del impuesto

el más interesado lo conocen ustedes en el establecimiento de esta medida debido seguramente al mayor impacto de turismo que recibe es el de nuestras capitales

donde se han aprobado varias mociones solicitando la creación por parte del gobierno vasco de esta medida la última por unanimidad el pasado mes de julio pero el debate lleva años abierto no solo en donostia donde el partido nacionalista vasco y el partido socialista

a pesar de no verlo claro en un primer momento ahora

y hasta la han anunciado a bombo y platillo durante la semana pasada el debate como decía lleva años abierto no solo en donostia ni tampoco solo en gipuzkoa cuyas juntas generales también acaban de instar

sino que es un debate con el que llevamos unos cuantos años a nivel autonómico lo hemos discutido en esta cámara en esta

coalición en el año dos mil diecisiete es un debate en nuestra opinión donde unas y otras instituciones se han ido pasando la pelota y mareando la perdiz con diferentes argumentos y excusas casi todo el mundo se muestra favorable a la tasa turística o favorable conceptualmente que diría

pero nadie acaba de poner encima de la mesa la iniciativa que la haga real en nuestra opinión esto se debe a que nadie se atreve a llevarle la contraria

a la medida bien nosotros sí nos hemos atrevido

en los ayuntamientos y territorios que están interesados y que vienen reclamándola de un tiempo a esta parte primero lo intentamos vía proposición no de ley como saben ustedes en el año dos mil diecisiete para que fuera el gobierno el que

pero finalmente tras la opinión de la nueva

más bien contraria al establecimiento de esta tasa pensamos que es el momento de traer la proposición de ley a debate a riesgo

de no salir en esta ocasión la iniciativa para la implantación de dicha tasa por parte de los ayuntamientos que así lo consideren oportuno algo en lo que hemos coincidido los diferentes grupos se precisa de la creación de normativa foral en aquellos territorios históricos en los que se encuentran dichos municipios y dicha normativa foral precisa de la creación de la figura legal impositiva por parte del parlamento vasco

habilitaría esta figura legal sabemos que hoy el parlamento

turística con el voto contrario a la misma de los partidos que respaldan al gobierno partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi en nuestra opinión esto no solo es contradictorio con las posiciones mantenidas por los responsables institucionales de estos mismos partidos en la diputación de gipuzkoa y en el ayuntamiento de donostia

y supone por lo tanto en nuestra opinión un cambio de orientación en el propio gobierno sabemos que la actual consejera como decía es contraria a la tasa turística y ya la ha descartado este cambio de orientación en el gobierno no se debe lógicamente a la mera opinión personal de la consejera o así lo creemos

o mejor dicho de la patronal del sector que es contraria a esta medida porque entiende que les perjudica para nuestro grupo esta medida que proponemos responde al interés

pero pensamos que permite que la tasa pueda ponerse en práctica en aquellos municipios y territorios que la reclaman sin afectar a quienes no la reclaman repercutiendo por lo tanto de manera positiva en los servicios públicos por lo tanto en nuestra opinión la medida responde al interés general y eso es lo que nos motiva a traerla hoy a debate

en este caso de la patronal de un sector pensamos que el interés general debe primar y no

pensamos que respaldar el inicio del trámite de esta proposición de ley es respaldar el interés general pensamos que oponerse a tramitar esta ley

poner por encima el interés particular de un sector por encima del interés general en la mesa de turismo el

estudiar la cuestión comenzó a plantear a los diferentes agentes

de avanzar en una ley en el parlamento vasco para establecer la tasa turística

encontró según podemos leer en las actas de la mesa de turismo con la posición contraria del sector con la posición contraria no por exactamente las mismas razones

y de álava y con la posición favorable de la diputación de gipuzkoa pero lo cierto es que el anterior consejero el señor retortillo planteó en aquella mesa

pero planteaba claramente ir hacia adelante con esta cuestión pensamos que lo que ha pasado desde aquella reunión en adelante es que ha pesado más y la opinión de uno de los agentes que es el de la patronal del sector que otro tipo de opiniones y la verdad es que lo lamentamos porque creemos

permitiría que aquellos ayuntamientos que tienen mayor afección del turismo y que además vienen reclamando por esta razón poder poner en marcha esta tasa

sin que el resto de ayuntamientos se vean obligados a implantarla por lo tanto pensamos que es una medida buena y que es una medida que no perjudica a nadie y pensamos que en algún momento esta medida acabará saliendo adelante

a través de esta proposición de ley pero nuestro grupo parlamentario y el conjunto de los partidos de nuestra coalición vamos a seguir insistiendo en esta cuestión en las tres

presidenta señor hernández como usted mismo ha dicho hace ya dos años que trajeron este tema hace dos años este parlamento aprobó una cosa que era que se pongan de acuerdo las administraciones contando con eudel con los ayuntamientos cosa que su proposición de ley no hace hombre no deja de ser curioso que españa que es uno de los países más turísticos del mundo que

turistas al año el doble de la población de todos los españoles solo haya dos comunidades autónomas donde tengan impuesta esta tasa ya desde hace algún tiempo nadie sabe que ha resuelto esa tasa

salvo recaudar más no los ayuntamientos la generalitat en su caso de cataluña y en su caso de baleares

y esto lo sabemos todos y el argumento a ver aquí se dice un argumento que es peculiar

porque su argumentación en la exposición de motivos y aquí hoy nos dice es que viene un turista

usa medios de transporte genera basura pero lo pagan o qué pasa que un turista no paga el autobús si se monta

los establecimientos de hostelería claro que lo paga

las tasas municipales oiga y los ingresos generan ingresos las administraciones vascas recaudan más dinero gracias al turismo que es una de las peculiares que se porque yo a ver yo soy de bilbao

por los gastos que le generan sino que además se dedica a intentar hacer eventos en bilbao que vengan congresos que vengan partidos de rugby de fútbol de lo que sea

que se genere más dinero y obtiene más ingresos y usted quiere gravarlo no sé por qué o para qué porque lo que usted propone no es eso ni siquiera grava eso su proposición de ley sabe usted lo que grava

y me voy al artículo que usted plantea en su proposición de ley

esto es lo que usted propone gravar su proposición de ley yo no me voy a extender mucho porque este debate ya lo hemos tenido en varias ocasiones pero sí le voy a decir una cosa este es un tema de competencias

y aquí hay tres administraciones que tienen regulaciones distintas y se regulan los impuestos de forma distinta aquí juega el concierto económico

para regular lo que dice el concierto económico no otras cosas

que da capacidad a este parlamento para crear impuestos nuevos

funciona la ley de régimen local por cierto ya que van a estar ustedes en el gobierno de españa modifíquela para que en toda españa el ayuntamiento que quiera pueda crear una ordenanza o una tasa

esa sería la vía lo que no es la vía es lo que ustedes plantean porque usted nos plantea aquí que aprobemos una ley que no se cumple en función de lo que quiera cada ayuntamiento y eso no es posible o creamos por ley un impuesto y se aplica en toda la comunidad pero usted lo que no puede decir luego es

viene a decir es que los ayuntamientos modifiquen el impuesto

las ordenanzas fiscales de los municipios vascos podrán modificar los elementos y cuantificación del impuesto que regula la ley oiga esto es una broma qué clase de ley nos propone que aprobemos aquí

legisla nada una que dice que son los ayuntamientos los que van a legislar pues eso no cabe aquí lo que cabe

el del mal llamado canon del agua que es otro impuesto autonómico eso sí cabe se estará de acuerdo o no pero cabe lo que no cabe es plantear aquí vamos a aprobar una ley de un impuesto pero los ayuntamientos decidirán si se aplica o no se aplica o cómo se aplica o cuándo se aplica

lo que usted nos ha traído hoy aquí como proposición de ley y lo sabe porque nos ha traído exactamente lo mismo que nos trajo hace dos años como proposición

y ahora le ha dado la forma pues ha copiado lo que han hecho por ahí algunos pero mal pero mal y desde luego como usted comprenderá por mucho que usted diga que las juntas generales aprobarán en el plazo de seis meses

lo que usted quiera eso no va a ser así eso no va a ser así porque este parlamento no tiene esta capacidad para hacerlo y además en segundo lugar no hace falta porque la norma general tributaria de cada territorio se aplica a

no se refiere a este impuesto de esta forma este de esta forma y este de esta forma es genérico para todos los impuestos y mire no le vemos ninguna utilidad salvo recaudar más pero claro no sé cuál es el problema que usted ha visto para que traigamos esto pero estoy seguro de que usted está seguro de que hay un problema y el problema la arregla

y ya está arreglado el problema ahora si el problema es que vienen muchos turistas que gastan mucho no les cobre un euro cóbreles cien

porque de qué se trata que vengan más turistas o de que vengan menos para qué es este impuesto y para que se lo quede el gobierno vasco

porque le recuerdo que transportes basuras y tal está regulado normas municipales

esas tasas que se pagan a cambio de un servicio municipal a cambio de un servicio municipal y todos las pagamos unos más y otros menos eso también es verdad y yo sin más pues creo que está claro que

muy brevemente solamente para responder al señor damborenea que al menos ha tenido el detalle de explicar su posición contraria

que compartimos y que por eso traemos la proposición de ley para aclarar

muchas veces en estos debates se ha pretendido que quienes defendemos esta medida se ha pretendido interpretar que estamos en contra del turismo que criticamos o que criticamos las bondades y los efectos positivos que puede tener el turismo en nuestra comunidad autónoma desde luego esa no es la posición de la coalición elkarrekin podemos para quienes el turismo es un sector más y es un turismo que evidentemente tiene afecciones positivas

autónoma y me parece importante aclararlo porque demasiadas veces se utiliza la polítiquería para intentar pretender que la opinión pública considere que nos estamos oponiendo al turismo y esto no es así

efectivamente el turismo genera ingresos y eso es bueno creo que he dicho y eso es bueno nosotros no nos oponemos a que haya turismo lo que sí pensamos

regulados y pensamos que la tasa turística es una buena medida para las cuestiones que yo he planteado porque sí ya hay impuestos que pagan los alojamientos cuando pagan basura cuando agua etcétera pero el turismo tiene un impacto que aumenta en determinadas localidades aumenta de manera considerable el gasto que se hace en esas cuestiones y ayuntamientos como el de donostia aunque este último año no ha sido así pero en el anterior periodo de tres años las vecinas y los vecinos

de una manera unos porcentajes muy elevados y una parte importante de ese impacto tiene que ver con el turismo y por lo tanto a nosotros sí que nos parece que esta medida ayudar también a paliar esas cuestiones y desde luego también sería una medida

reinvertir una parte de ese dinero en mejorar la calidad de nuestro turismo en redistribuir el turismo dentro de nuestra comunidad y potenciar aquellos sitios que en estos momentos tienen menor impacto de turismo pero que desarrollando una política adecuada podrían tener también esas bondades de ese turismo de las que hablamos la proposición de ley

que está bien redactada y que es acertada también por supuesto no nos creemos con toda la verdad y desde luego sabemos que es una proposición de ley y que tiene un trámite parlamentario donde se pueden despejar cuestiones y donde se puede adecuar entre todos los grupos como sería pero pensamos que la tasa turística es positiva y creo que el partido popular es el único grupo que realmente está en contra de esta figura

que el resto de grupos que de una manera u otra se han ido posicionando favorables a la tasa turística con matices o por territorios finalmente lleguen a dar con la fórmula para ponerla en práctica porque usted me dice a mí

es la transacción que pactaron ustedes y que mi grupo votó en contra no obstante se pidió que las instituciones se pongan de acuerdo no está en manos del grupo parlamentario de elkarrekin podemos ni de ninguno de los partidos de nuestra coalición que no gobernamos en ninguna de esas instituciones ni en los principales ayuntamientos afectados ni en las diputaciones

en la comunidad autónoma pero lo cierto es que con este tema llevamos ya unos cuantos años donde o no se ponen de acuerdo o

han sido conocidos todo tipo de informes la diputación de gipuzkoa recientemente creo que hace una semana o dos ha pedido al gobierno vasco que habilite

en julio reiteradamente porque lo lleva haciendo desde hace varios años y por lo tanto me parece que el conjunto de organizaciones políticas en las administraciones con responsabilidad de gobierno no están respondiendo a una necesidad nosotros

y la traíamos a sabiendas de que no iba sale salir adelante

también su parte no voy a decir que no trabajen pero llevan ya muchos años mareando la perdiz y dando vueltas a esta

señor hernández me pone usted otra vez el ejemplo y mi me dice se ha subido las tasas de las basuras de forma desproporcionada a lo mejor resulta que los grupos municipales son unos jetas porque

subir la tasa de basuras a los establecimientos hosteleros y hoteleros

si de verdad les preocupa verdad el tema de turismo en su mano tienen mañana lo pueden aprobar en vez de subir a todos los vecinos

causa mucho consumo en los bares en los restaurantes en los hoteles

no sé por qué no lo hace ningún ayuntamiento por qué no lo hacen qué estamos discutiendo aquí de verdad segundo usted dice generan generan ingresos hombre claro que generan ingresos en dos mil diecisiete según usted más de cuatro mil cuatrocientos millónes de euros

en impuestos las diputaciones forales y el dinero de las diputaciones forales más del cincuenta por ciento dónde va a los ayuntamientos a los ayuntamientos o sea ya están recibiendo los ayuntamientos dinero del ingreso que genera el turismo

lo que pasa es que evidentemente hay sitios más turísticos que sí pueden vivir del turismo y otros que no que es la mayor parte del país vasco porque es que el turismo aquí es

incipiente en todo el país vasco y en algunas zonas inexistente como para poner un impuesto genérico para todo el país vasco y le repito

si usted quiere que un ayuntamiento pueda poner una tasa o un impuesto modifican la ley de régimen local y dan la posibilidad de que los ayuntamientos puedan inventarse ese impuesto si quieren o no y que lo regulen

de régimen local para todos los ayuntamientos no solo del país vasco de toda españa de toda españa que ya es casualidad que en andalucía nunca se haya aprobado eso que en valencia no se haya aprobado eso que en canarias no se haya aprobado nada semejante y viven bastante más que nosotros del turismo

sí egun on los socialistas vascos hemos votado en contra de la proposición de ley que había formulado elkarrekin podemos

con respecto al impuesto sobre estancias turísticas en el país vasco por los siguientes motivos en primer lugar

y en segundo lugar porque esta iniciativa no respeta el acuerdo que adoptamos en esta cámara cuando aprobamos en septiembre de dos mil diecisiete una enmienda transaccional que suscribimos

y populares vascos por la que se instaba al gobierno vasco a establecer una interlocución con eudel para abordar una reflexión acerca del establecimiento de la llamada tasa turística para su aplicación en el ámbito municipal y a analizar con las administraciones vascas y con los agentes del sector turístico

de la implantación de la llamada tasa turística así como sus características el procedimiento a impulsar en caso de resultar oportuno su establecimiento

una serie de acciones en primer lugar se elaboró un dictamen sobre el marco legal vigente para la creación de un impuesto turístico

ese dictamen se presentó a la mesa de turismo el treinta de noviembre de dos mil dieciocho y en dicha sesión tanto los representantes del sector como las distintas instituciones participantes manifestaron su opinión al respecto eran opiniones que fundamentalmente fueron divergentes

a las instituciones y que mayoritariamente planteaban un criterio desfavorable por parte

también se solicitó un informe a la hacienda vasca que analizase las diferentes alternativas y ámbitos en los que podía establecerse un impuesto sobre pernoctaciones o la mal llamada

posteriormente se celebra una reunión entre el gobierno vasco representado por la consejera de turismo comercio y consumo con representantes de eudel y con las instituciones y según consta en el acta se plantean diversas alternativas y ámbitos en los que podría establecerse un impuesto sobre pernoctaciones

la creación de un nuevo impuesto municipal por parte del estado la creación de un impuesto foral de carácter territorial la creación de un nuevo impuesto dentro del ámbito de los impuestos locales la creación de una tasa municipal o bien incorporar un recargo en uno de los cinco impuestos municipales

y la representación institucional local no tiene un criterio unánime favorable a la implantación de este impuesto de pernoctaciones

tanto los representantes del ayuntamiento de bilbao como los representantes del ayuntamiento de gasteiz no veían en cambio la necesidad

y la representación de eudel coincide con el gobierno vasco en que la realidad de los ayuntamientos es muy diversa y que salvo municipios con mayor aceptación desde un punto de vista turístico como puede ser el de donostia san sebastián los demás no ven la necesidad de implantar de forma genérica para todo euskadi un impuesto de estas características sin embargo eudel además

explorar la vía oportuna para poder articular en sus municipios

y ya para acabar el pasado once de diciembre se celebró una reunión de la mesa de turismo de euskadi en la que la divergencia de posiciones y las valoraciones sobre la implantación de este impuesto eran manifiestas con una clara mayoría de oposición a su implantación en estos momentos y es por eso que el gobierno vasco entendiendo que los criterios de oportunidad y de necesidad manifestados en las diversas reuniones y por diferentes agentes es cuando el gobierno vasco rechaza la posibilidad de implantar un impuesto de pernoctaciones

la coordinación y la colaboración interinstitucional sino que también podría producir disfunciones en la política de ordenación del turismo cuyo diseño se pretende que sea coordinado y consensuado con las instituciones vascas y con el sector turístico y esta posición del gobierno vasco ni obstaculiza

por parte de las diputaciones forales y de las instituciones locales que consideren positiva su implantación territorial o local como es el caso o pudiera ser el caso

histórico de gipuzkoa que analizó en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve en una ponencia sobre turismo entre otros asuntos esta cuestión de la tasa y manifestó desde entonces ya su posición favorable por eso los socialistas vascos hemos votado en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley

es menos frívola a otra historia de roma que me venía a la cabeza cuando le escuchaba a usted

con un emperador el emperador vespasiano cuando

calígula y demás despellejó a todos y cuando llegó a vespasiano que había sido una especie de paréntesis en esa historia cruenta de los primeros emperadores romanos

entonces se hizo eco de la fama que tenía vespasiano de ser un tacaño un emperador tacaño y vespasiano tomó una decisión que era la de tasar la orina que se vertía en las letrinas

entonces bueno eso generó una cierta sorna en roma diciendo que hasta la orina iba a estar tasada y cuenta

de oro con el tributo recaudado a cuenta de tasar la orina vespasiano la olió y dijo non olet

si no vamos a producir ningún efecto pernicioso y vamos a recaudar dinero

es injusto y discriminatorio imponer solo a quienes pernoctan un gravamen para sufragar los efectos derivados de quienes solo nos visitan

donde están representados el gobierno diputaciones y ayuntamientos en dicha reunión se presentó el informe realizado por el departamento de hacienda al gobierno vasco referente al tributo sobre las estancias

eta gaiaren funtsa azaldu ondoren lege proposamenaren muinara pasatuko naiz esta proposición de ley permítame la expresión

nos plantea un impuesto autonómico de aplicación municipal voluntaria para ser de aplicación municipal voluntaria debería ser un impuesto municipal no necesitaríamos un impuesto autonómico

esta proposición de ley no es clara no define tres aspectos fundamentales

no define qué institución va a gestionar el impuesto no define qué institución va a inspeccionar el impuesto y no define qué institución va a recaudar dicho impuesto baina egia da

lehenengoa un impuesto aprobado por las juntas generas de cada territorio histórico

y pudiera entenderse que precisaría de su concertación con la administración del estado probablemente sería una tramitación bastante controvertida eta bigarrena un impuesto estatal

dos barra dos mil cuatro de cinco de marzo reguladora de las haciendas locales e incluir un impuesto facultativo sobre estancias en alojamientos turísticos una vez hecha la modificación de dicha ley

lo podrían incluir en sus ordenanzas fiscales el debate sobre este impuesto estatal no sería nuevo en el acuerdo del consejo de ministros del diez de febrero de dos mil diecisiete se constituyó la comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local

año se publica el informe de la comisión en este informe se justifica el establecimiento de un impuesto sobre estancias turísticas en ámbito local a través de la ley de base de régimen local en vez

los turistas son soportados por las entidades locales laburbilduz

gracias señora presidenta señor consejero señoras consejeras señorías interpelábamos al señor

segunda incluida en el proyecto de ley de presupuestos dos mil veinte disposición en su enunciado dice modificación de la ley uno barra dos mil seis de veintitrés de junio de aguas en relación con la regulación del canon del agua

se modifica el capítulo ocho el régimen económico financiero este capítulo tiene trece artículos se modifican sustancialmente

se modifica el tributo se modifica la base imponible ahora es el consumo luego va a pasar a ser la captación el tipo impositivo el momento del devengo

y se modifica el régimen de exenciones y bonificaciones como les decía una modificación importante que consideramos desde el grupo popular que el procedimiento para tratar una modificación de esta envergadura es pasando por el órgano legislador que es

como ya hemos modificado esta misma mañana un artículo de la ley de caza con el objetivo de solucionar un problema que suscitaba la redacción de dicho artículo

estas modificaciones urgentes por esta cámara y hay métodos para hacerlo porque fíjese el señor consejero vino a esta cámara a presentar la ley de presupuestos lo que afectaba a su departamento y se le olvidó

a preguntas del grupo popular no sé si era la prueba para ver si nos leemos el presupuesto igual era la prueba solemos hacer nuestro trabajo todo lo bien que podemos y que

es una iniciativa que viene fundamentalmente del departamento de hacienda pero que desde medioambiente se comparte plenamente esta propuesta y que estaba totalmente de acuerdo con la iniciativa de hacienda luego claro cuando ya pasamos a la interpelación ya corrige la respuesta no y dice no es una reflexión

y la agencia vasca del agua hombre ya hemos modulado verdad la respuesta y dice bueno y

el cumplimiento y la eficacia de la gestión del agua después de diez años aprobada la ley y una modificación para qué para recuperar costes de los servicios relacionados con el agua y el valor real de lo que cuesta todo

actualmente no están sujetos a canon los usos domésticos los agropecuarios o las pérdidas y fugas incontroladas de las redes de captación y suministro porque el hecho imponible es el consumo real o potencial y simplificando el volumen de agua que sale del grifo y claro esta situación llega a solo a un catorce coma seis por ciento del consumo que solo un catorce coma seis y que con la modificación

por el ochenta y cinco por ciento de lo captado en toda esta justificación alguien ha oído algún término medioambiental alguna precisión

solo caja este es el argumento aumentar la recaudación y efectivamente

va a aumentar de lo que estamos recaudando ahora a lo que se prevé en un doscientos treinta y tres por ciento y dice en cumplimiento

claro pero es que vino a comisión también el señor martínez de cabredo y fue preguntado

y la respuesta es para nota para nota el cálculo real del daño pues es muy complicado no sabemos hacerlo lo hemos consultado en varios organismos

no es fácil calcular el daño por la captación no sabemos hacerlo no sabemos asociarlo a un importe económico es un tema muy complicado oiga y yo pregunto si no se sabe hacer el cálculo si no sabemos cómo

a la captación de qué viene este canon si no saben hacerlo se les ha ocurrido ah

a base de sensaciones tengo la sensación de que el daño que se produce es este porque si no saben hacerlo

esto es muy fuerte este gobierno no para de innovar es una cosa tremenda no hay un informe ni criterio ni nada medioambiental que avale esta modificación

no hay un informe que establezca un sistema de gestión no hay una sola iniciativa para reducir las pérdidas de la red esas que tanto le preocupan o no porque claro yo ya pienso que no les preocupa por qué

más aumenta la captación más aumenta el canon las pérdidas aumentan la captación con lo cual se resume en

a cobrar pues eso es no hay un informe

los consumidores pagamos el agua hace muchísimo tiempo

en función de las ordenanzas de los entes gestores constituye el hecho imponible de la tasa de abastecimiento de agua

también está la tasa de saneamiento cuyo hecho imponible es el vertido real o potencial de las aguas residuales provenientes del suministro público o privado los entes gestores los ayuntamientos los consorcios las juntas administrativas llevan muchos años en esta comunidad autónoma

de los consumos precisamente para impulsar el ahorro de agua

se van a hacer ustedes los responsables de la gestión del canon porque ahora resultará que además de imponernos un impuesto tenemos que cargar con los costes de la gestión y esto sería ya pues no para nota

todo esto apoquinando cargando la responsabilidad en las gestiones de quién de los entes

los usuarios y le repito años los entes gestores regulando las tasas de agua primando el buen uso y fomentando prácticas de ahorro del agua y aquellos que más consumen pues efectivamente más pagan con cuántas variables

y ustedes no han pensado no han expuesto un criterio medioambiental a esto no no piensan

cuando la base de la gestión del agua debe ser garantizar el agua como un derecho que es

le recuerdo que en dos mil diez la asamblea general de naciones unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento y las administraciones en ese reconocimiento utilizarán los recursos técnicos y financieros para proporcionar un suministro necesario de agua potable y saneamiento saludable limpio accesible y asequible para todos esto a ustedes no les ha preocupado no he visto una exención para que aquel que no sé tenemos

ustedes tienen un bono para quien no pueda pagar esta tasa

pero lo que no dice en ningún sitio la asamblea general de naciones unidas es que

a costa de los ciudadanos se olvidan del recurso natural se olvidan del derecho humano al agua y se centran exclusivamente en el interés económico

el hacer caja con los recursos naturales a costa de los ciudadanos y yo me pregunto los objetivos medioambientales la mayor eficiencia el consumo responsable la buena gestión del agua

ustedes no ustedes caja para esto no necesitamos ni ura ni estas alforjas

lo que implica lo que afecta a los consumidores a los usuarios a los entes gestores

y a los distintos sectores en definitiva que tengan un tránsito lógico por esta cámara y que profundicemos en los objetivos que queremos conseguir y en los métodos y medidas que se deben establecer algo lógico algo normal

a la trampa por la puerta de atrás en una disposición de la ley de presupuestos sin anunciarla en su

que no la anuncia que si sale es porque se lo preguntamos nosotros si no pasa desapercibido eso es ocultar información eso es la no transparencia

usuarios los consumidores y los ciudadanos a ustedes les interesa hacer caja y ese es el objetivo de esta modificación y por eso nosotros hemos presentado una moción en la que le instamos al gobierno vasco a que remita al parlamento

de la ley de aguas ustedes proponen que yo no estoy en contra de si hay que modificar o no lo que queremos es que tenga un tránsito legal claro transparente nítido que estemos todos informados los entes gestores los usuarios los consumidores

y que luego las mayorías decidan pero no esta dictadura que ustedes imponen y lo que pedimos es que se traiga esa modificación que eso que prevén de regular el canon del agua que está prevista en la disposición final y que

y aquellos que consideremos oportunos y que resolvamos en esta cámara con las mayorías que se suscite esa propuesta

sus criterios algo lógico y normal para eso venimos aquí y por eso es lo que les pido que voten a favor

a debatir sobre la moción la proposición no de ley que nos trae el partido popular sobre la modificación del canon del agua me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la fiscalidad verde porque en el fondo el canon del agua es forma parte de eso que llamamos la fiscalidad verde y que al final todos en esta cámara todos y todas décimos defender la fiscalía verde al final tiene un doble objetivo por un lado gravar un comportamiento insostenible con el medio ambiente o el uso

y por el otro lado recaudar fondos para la mejora o la restauración del medio ambiente fundamentalmente en el caso de los impuestos y tasas finalistas como es el caso de este canon del agua

se vio se estimó oportuno introducir una herramienta de fiscalidad verde como era el canon del agua y nuestro grupo

estábamos en la arena política entonces defendíamos

kanona onartu zenetik eta gure ustez bada garaia eguneratzeko es hora de actualizarlo es hora de actualizarlo y no de retrasar su actualización teniendo en cuenta que el propio director de aguas

que en todo caso esta tasa a pesar de que se apruebe ahora va a entrar en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno estimamos que retrasar más su puesta en marcha su modificación no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido alude el partido popular a la ausencia

más o menos será más o menos completo como casi todos los que hace el gobierno pero estar está por qué entendemos nuestro grupo que sí es el momento ahora de actualizar

que se han visto por parte del gobierno y que se pusieron de manifiesto también en esa comparecencia del director del agua

se están emitiendo miles y miles de recibos a las familias y además tenemos con que solamente un catorce por ciento del agua está

estamos haciendo un uso parcial y discriminatorio de un impuesto que debería de ser justo y equitativo y hay otra cuestión que en estos últimos trece años ha cambiado respecto a cuando se aprobó el canon del agua y es la emergencia climática y algunos de ustedes dirán ya está otra vez el señor becerra con la emergencia climática qué pesado pero la realidad

ahora hoy en día de inundaciones de trombas de agua de efectos del cambio climático digamos ligados a temporales llegarán sin duda llegarán episodios de escasez de agua dulce nos llegarán también a euskadi como ya lo tuvimos en el pasado y llegarán episodios de estrés de recursos hídricos ríos y arroyos y ya están llegando todos los veranos euskadi es una comunidad con una alta dependencia de un único sistema de abastecimiento

y depender tener todos los huevos en la misma cesta nos hace muy vulnerables de cara al futuro

y no podemos esperar uno ni dos años más nos urge fomentar el ahorro del agua

y nos urge castigar el derroche para que con todas esas medidas podamos incrementar el caudal de nuestros ríos y arroyos no solo el caudal ecológico no solo el caudal mínimo sino el caudal que habitualmente llevan

ha dicho la señora lópez de ocariz y que es importante la de la progresividad de los impuestos porque a la fiscalidad verde

que no es progresiva que efectivamente todos y todas pagamos el canon del agua por igual tengamos los recursos que tengamos bien la ventaja del nuevo canon

y que posiblemente y que posiblemente provocará un incremento de las tarifas del agua posiblemente y eso hay que reconocer que sea así

apliquen unas tarifas unas tarifas progresivas

pero lo ideal sería que lo fuesen aplicando la no progresividad

desaparecerá es cierto

por fin se imputan las pérdidas por fin se imputan las pérdidas

que en nuestra enmienda no nos hayamos referido solamente a la cuestión del ahorro y la reutilización del agua sino a la cuestión importante también

a considerar dentro de las inversiones que apoya a día de hoy en materia abastecimiento y saneamiento de aguas también las inversiones

de nuestras redes de abastecimiento para que no tengan que afrontar los entes gestores

esta carga sino que el gobierno vasco con criterios objetivos y transparentes por supuesto se implique en esta tarea al futuro pero pero no consideramos que la imputación de las pérdidas sea algo que haya que achacarle al gobierno vasco sino que nuestros grupos políticos todos ellos tendremos que actuar

y el partido popular está y elkarrekin podemos está y el resto de grupos de la cámara estamos

se comporten con la suficiente equidad como para no

el problema a las familias que es lo que en última instancia nos preocupa tanto a la señora lópez de ocariz como a nuestro grupo eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

gracias presidenta y buenos días a todos y a todas primero le diría a la señora lópez de ocariz que creo que el tema habría que tratarlo con menos frivolidad

y lo que se hizo en esta cámara con hablar de lo que se va a pagar a través del canon del agua recordándole que esta parlamentaria presentó veinte iniciativas a la pobreza energética y en veinte ocasiones a usted le pareció siempre igual de mal por no hablar y no querer recordar

con el debate enmiendas posicionamiento y votación de esta ley que también incluía como todos sabemos el canon del agua está bien preocuparnos ahora pero quizás

lo que cada partido político entendía que era mejor y no el no por el no que fue la posición del partido popular en aquel momento de debate de aquella ley ya mi intervención va a ser casi repetir de otra manera con otras palabras lo que ya le explicó el señor arriola pero que a usted no termina de convencerle

con el director de la agencia vasca del agua y con cualquier propuesta decisión debate adjudicación todo lo que tiene que ver con ura usted lo pone en cuestión

pues un mantra y una bandera que usted ha tomado a lo largo de esta legislatura

y va a aceptar algunas de las cosas que en aquel momento le dijo el señor arriola y que yo hoy voy a intentar repetirle quizás de otra manera

en relación con el canon como le digo surge de un amplio análisis de aplicación y gestión del mismo análisis que a usted no le vale informe que usted niega y que

es una modificación técnica tributaria de la ley de aguas que no afecta a los principios ordenadores de la regulación tal y como se establecía en dicha ley que no son otros que la contribución a un uso sostenible de los servicios públicos del agua a ver si esto es medioambiental o no y a la contribución a la recuperación de los costes en que se haya incurrido

ambientales de infraestructuras y los costes de recursos donde además las cantidades recaudadas que se dedican a la prevención de la contaminación la financiación de gastos de inversión así como para la consecución de un buen estado ecológico de la masa del agua a ver si a usted le parece que esto tampoco es un criterio medioambiental

y la misma ha sido ampliamente informada y discutida con las principales entidades gestoras del agua del territorio como consorcios y mancomunidades a los que hay que tener en cuenta su opinión

y siendo básicamente una modificación tributaria lo más adecuado era su tramitación mediante la incorporación

habló de esto o no en la comparecencia no se trata de ocultar porque está en el documento está en el proyecto que usted recibió que usted pudo estudiar y que usted está claro que analizó

en esta cámara por lo tanto no busque más allá de lo que no hay usted preguntó usted fue respondida por lo tanto nada de ocultar no hay opacidad no hay nada que el grupo socialista vaya a defender en algo que usted pretende ver por lo que entendemos que la moción del partido popular

y en definitiva congelar una modificación que se considera necesaria y que puede impulsar una concepción de la gestión del agua en euskadi desde la visión del ciclo completo del agua intentaré explicar cuáles son algunos de los motivos y los efectos de la modificación propuesta que ya son conocidos por todos ustedes y que además ya sé

la modificación propuesta del capítulo ocho de la ley de veintitrés de junio de aguas se basa en los siguientes motivos avanzar en el cumplimiento del principio de recuperación de costes medioambientales

acercar de acuerdo con dicho principio el hecho imponible al impacto producido sobre el medio simplificar los trámites administrativos y macerar la gestión tributaria por cierto

una y otra vez porque entendemos que el ciudadano y todos aquellos que lo necesiten deben obtener todas las facilidades por parte de la administración y por último fomentar el uso eficiente del agua y su reutilización el canon del agua

fue creado de acuerdo con este principio comunitario de recuperación de costes ambientales a los que usted se ha hecho referencia de modo que las cantidades recaudadas se dedican a la prevención de la contaminación la financiación de gastos de inversión y como le he dicho antes recuperar el estado ecológico de la masa de agua

persigue básicamente modificar el comportamiento de los agentes

actuaciones tendentes a la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica algo de lo que también muchas veces hablamos pero cuando queremos buscar la herramienta

todos teníamos claro qué es lo que se pretendía cuando se apoyó por quienes en aquel momento dimos el apoyo y ahora parece que todo se pone en cuestión no sé muy bien si es por quien lo gestiona

por lo que efectivamente pretende sin embargo de acuerdo con la normativa vigente hasta el momento no todos los usos del agua contribuyen a recuperar

o a los efectos adversos sobre el medio acuático con la modificación normativa propuesta que incluye una nueva definición del hecho imponible y la reducción de exenciones y bonificaciones se pretende avanzar en el cumplimiento de los objetivos que la ley establece para el canon del agua

del tributo por tanto defendemos como no puede ser otra manera la modificación que propone el gobierno por necesaria por seria y por rigurosa se centra en la captación y no en el consumo con lo que de facto ya está penalizando las pérdidas que se pueden realizar por los administradores y se decide llevar a los presupuestos por agilidad simplificación y porque es una modificación técnica no sustancial

de instalaciones en lo que tiene que ver con la gestión del agua como en este caso y a lo largo de esta legislatura hemos hablado los colectores de busturialdea el saneamiento de oion de agurain y de pasaia

el ciclo completo del agua y desde luego y no dudamos ha de evolucionar a una gestión integral del agua de máxima eficacia y eficiencia en todos los territorios por lo tanto queda claro cuál era el objeto que tenía el gobierno cuando lo plantea

y queda claro que se entiende que es la mejor forma para agilizar simplificar y desde luego no congelar aquello que el partido popular dice pretender pero que con su iniciativa parlamentaria quedaría a llevar a cabo un proceso mucho más largo en el tiempo de lo que

que se van a aprobar en próximas semanas por tanto votaremos en contra de la propuesta de la señora lópez de ocariz y los grupos que sostenemos al gobierno

votar a favor o en contra de la modificación sí o no pero ante la enmienda planteada por el señor becerra y por el grupo podemos la apoyaremos y votaremos de forma favorable nada más muchas gracias

si son conscientes del lío que van a armar y de los prejuicios que van a provocar con la propuesta de modificación de canon

que van a intentar aprobar como bien ha dicho la señora lópez de ocariz a través de la puerta de atrás de los presupuestos siendo esta una modificación sustancial

beraz galera gehiago izango dituzte canon ordainketa gehiago etorriko da eta abar eta abar es decir mete en una espiral diabólica al pequeño gestor

que no ha explicado cómo va a distribuir esa recaudación no hay un estudio económico mínimamente detallado

así que por ejemplo no se toma en cuenta que la pérdida la reducción de la pérdida de agua en el ámbito rural es mucho muchísimo más complicado y para los gestores menores

que va a venir con la modificación laburbilduz laburbilduz si la idea

que pagar y eso no se terminó de controlar no se pudo hacer efectivo ahora se dice bah ahora los despilfarradores son los gestores

directamente y así los vamos a penalizar a quién va

evidentemente a todos los pequeños gestores con los que no se ha hablado y de los que no se ha pedido ninguna opinión como ya se nos ha dicho

sino a quien por su estructura territorial y poblacional este más agrupado y más densificado

obligarlos a tomar la decisión de subir mucho los precios o dejar de invertir y creo que esa no debía de ser la idea eta gainera guzti hau

eztabaida legebiltzar honi lapurtuta eta ur kudeatzaile gehienei iritzia eskatu gabe y habría que hablar y no se ha hablado del destino del dinero que se va a recaudar y de las necesidades que hay según la directiva marco del agua el destino

mejora del estado de masas de agua sobre todo esto se ha hablado mucho en este parlamento

en el año dos mil diecisiete en octubre que se aprobó por unanimidad

en la que se hablaba de hacer un plan integral para la mejora del estado de las masas de agua superficiales en el país vasco que se debía presentar en un año en octubre del dos mil dieciocho estamos en diciembre dos mil diecinueve y no se ha hecho el gobierno no ha hecho los deberes en este tema

de inventariar digamos todas las necesidades que había

medidas se hablaba de un calendario de ejecución de las medidas planteadas todo esto no se ha hecho no se ha hecho y a última hora como el estudiante que estudia en el último momento para aprobar un examen nos cuelan

el debate parlamentario hurtando las comparecencias que pudieran venir de aquellas personas usuarios asambleas gestores que están

hemen remitir al parlamento la propuesta de modificación

ustedes ustedes están apostando por un modelo de gestión del agua basado en una gestión centralizada

que viene disfrazada como impuesto medioambiental va sobre todo en esta dirección va a sobre todo en esta dirección y no tiene un pase gure ustez

el problema de las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento que el señor consejero de que el señor director de ura cuantificaba en un veinticinco por ciento pues él solo no ahora

de las captaciones de ríos y de manantiales evidentemente sí sin lugar a dudas las captaciones de uso doméstico gozan desde hace diez años cuando se aprobó la ley y el decreto que lo desarrolló de una moratoria de facto que bueno que ni este parlamento ni este gobierno

una complejidad técnica y administrativa a la hora de llevarla a cabo porque hay miles de facturas pequeñas

no lo podemos afirmar tajantemente pero pudiera haber un cierto grado de picaresca por tanto

y que se consigue mediante esta modificación por tanto nuestro grupo considera que esta medida goza tiene todo el goza de sentido común porque en fin usted dice

pero no es hacer caja es recaudar es que se haga cumplir la ley y de hecho la realidad se puede ver siempre desde dos caras distintas porque en realidad lo que hace la tasa es bajar al cincuenta por ciento es decir la tasa baja al cincuenta por ciento baja a la mitad por tanto se puede ver

y usted también convendrá conmigo en que hay el mal vicio de dejar el grifo abierto lo que es gratis pues no se cuida de la misma forma por tanto es un canon que tiene que ver con esto que tiene que ver con cuidar

el estado de los ríos y en ir concienciando también en las captaciones pequeñas y medianas para que

un mayor una mayor conciencia medioambiental habla usted y también el señor otero de temas procedimentales la señora lópez de ocariz ha sido un poquito más

lo cierto es que ustedes a veces es fácil rebatirles porque de cada pecado tienen diez entonces el gobierno de rajoy usó la misma el mismo procedimiento en veintitrés enmiendas de ley

se hace este tipo de movimientos es decir modificar con una ley otra ley

y es cierto que en el caso del congreso a veces se hace con el ánimo

a la labor legislativa del congreso porque a veces se trata de esquivar el veto el posible veto del senado a veces se trata de esquivar debates que pudieran ser en este caso lo ha explicado bien técnicamente la señora rojo se cambia el cómo se aplica la ley no la esencia misma de la ley no no el espíritu no los principios rectores es una modificación tributaria que tiene perfecta cabida

en una disposición vía presupuestos y por tanto es algo que se puede hacer y es algo que se ha hecho y es algo que en el fondo esta cámara

en el fondo de la modificación el único que ha mostrado algún tipo de reticencia sobre el fondo es su grupo habla después de bonos de progresividad en la aplicación

una línea que cobrará el consorcio es decir confunde usted un poco los planos no si queremos hacer bueno bonificaciones a los usuarios porque no puedan pagar

pero desde luego no a través de esta modificación y le agradezco que haya cambiado el enfoque de una de sus críticas que es que antes decía que los usuarios van a sufrir el doscientos treinta y tres por ciento de su vida en su factura del agua le agradezco que hoy haya sido bueno haya hilado un poquito más fino y haya dicho que ese aumento es en el aumento de la recaudación de una recaudación

es verdad cinco millónes de euros sobre dos millónes es un porcentaje importante pero es que estamos hablando de que el quesito de las captaciones domésticas paguen a día de hoy

aguas que en su artículo cuarenta y uno que no se ha modificado que son los principios ordenadores dice

utilizadas y con la degradación del medio producido por su uso y será progresivo en función de la cantidad consumida

modifican el artículo siguiente y el siguiente y el siguiente este no el principio rector dice una cosa y los artículos que se derivan de esos principios rectores dicen lo contrario oiga ustedes mismos

pero debe ser por nuestro carácter rural ese que ustedes priman en la modificación de ley de turismo que han traído a esta cámara no en una ley de presupuestos

han hecho una proposición de ley ustedes y la traen a esta cámara

por qué no quieren ser igual de transparentes por qué no quieren darnos igual oportunidad que en ese caso lo podemos hacer en dos meses en tres tiempo suficiente hasta enero del dos mil veintiuno que dicen que van a aplicar ustedes esto tiempo suficiente no es retrasar nada es poner

paran esto porque aquí no quieren poner el foco de la transparencia

señor becerra me hablaba usted de fiscalidad verde elkarrekin podemos en esa transformación yo creo que ya le la fiscalidad que lo verde lo verde es para otear la parcela esa

lo verde lo dejan para eso para la parcela metros para regar van a tener que pagar eh es caro o sea

pedimos nosotros no solo estudio económico estudio socioeconómico porque no es igual un núcleo que otro porque las captaciones no están todas a la misma distancia porque hay muchas salvedades que atender y porque efectivamente la realidad de euskadi es muy diferente en unas zonas que en otras y por eso hace falta un estudio socioeconómico no la cuenta de la abuela que ha hecho la consejería

modifico la base imponible la captación es mayor póngaselo a siete

no hay otro argumento nunca dice otro argumento nunca se ha puesto encima de la mesa un argumento medioambiental nunca ahora ustedes pues se han convertido en plastilina sus principios han ido a la papelera han sacado los otros han cambiado de mochila vale pues ustedes mismos pero no me intenten convencer

que ustedes ponen aquí es pelín peregrino porque

al gobierno vasco que a partir de la fecha de aplicación del nuevo canon del agua contemple la posibilidad oiga

la reducción de las pérdidas de agua potable contemple la posibilidad de incluir

de acuerdo con que haya pérdidas claro más perdidas más canon a usted le va a venir bien más ingreso usted va a decir no mire pues no vamos a gastar aquí o allá

está en la caja y ya no se puede cambiar está en la caja y claro dice no

dinero o monedas los entes gestores como ha dicho señora ponen en el recibo al consumidor una línea más y que va a ser el canon ese de qué nos están hablando la verdad es que es una pena es una pena que lo que parecía que ustedes traían de positivo aquí pues ahora se lo han cargado y lo han tirado a la basura al final como les decía el otro día

y se han plegado a eso que ustedes denunciaban a eso que ustedes venían a limpiar que no
se han metido en el mismo fango que decían que estamos el resto nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

nuestro grupo no comparte ningún modelo de gobernanza con el gobierno y lo que no sé es cuál es el suyo porque ustedes no han enmendado no tienen ningún modelo de gobernanza aquí entiendo entiendo quizás el único que comparten es el que tiene el pp por eso van a apoyar directamente no compartimos el mismo modelo de gobernanza y precisamente por eso hemos hecho una enmienda donde décimos que algo que no que no señora lópez de ocariz que no es competencia del gobierno vasco que es la gestión

contemple la posibilidad de apoyarlo igual que apoya otras inversiones pero no es competencia del gobierno vasco eso se lo han dicho una y otra vez y a mí no me gusta que eso sea así pero es así las redes de abastecimiento no son del gobierno vasco por eso no le podemos obligar ni siquiera en una pnl al gobierno vasco

apoye esas inversiones pero sí que lo hemos dicho porque ese debate ya lo tuvimos que sea con criterios objetivos y transparentes precisamente para que no pase lo que está pasando

y los pequeños se quedan sin nada y ese es el modelo de gobernanza que sí compartimos con eh bildu y que ya lo hemos dicho en más de una ocasión y ese debate ya lo tuvimos

señora lópez de ocariz pide estudios socioeconómicos sobre este

que se nos genera con estos presupuestos me puede decir en los presupuestos de dos mil dieciocho que ustedes pactaron gracias a una reforma fiscal en las tres diputaciones

apoyaron para hacer aquella rebaja fiscal a las empresas me lo puede presentar pues esos son nuestros principios
y esos eran los que teníamos en dos mil dieciocho eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

gracias presidenta señor otero que si somos consciente del lío que vamos a montar con esto

absoluta en esta iniciativa que ha presentado porque el partido popular ha presentado una enmienda a estos presupuestos de supresión de esta disposición

con lo que hoy nos trae a este debate pero eh bildu qué ha hecho ha presentado esa misma enmienda que ha presentado el partido popular estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo

y ustedes cómo pretenden que se hagan las cosas por ciencia infusa porque por lo menos hay quien propone

pero eh bildu desde luego no ha planteado en ningún momento esto porque usted en su intervención ha defendido una cosa y la contraria ha defendido el canon pero va a votar que no ha defendido la

y si no vaya les invito a que repasen el debate de aquel momento en el que se aprobó este canon porque partidos que hoy forman parte de esa grada qué votaban y dónde estaban

casi en el dos mil veinte oiga que no y luego otra cosa esto esta inicia o sea esta propuesta que trae el gobierno qué es de lectura única sin posibilidad de enmiendas sin imposibilidad de debate o hay una probabilidad de debate porque esto se hace a través de una ley la ley de presupuestos es tan ley como otro tipo de leyes entontes ustedes podían haber propuesto una enmienda debatirla convencer votar y ganar

por lo tanto coherencia le tengo que reconocer a la señora lópez de ocariz pero en este caso a usted no ustedes quieren todo y luego dicen no es que hemos hablado con entes gestores y los demás no solo valen

con los que habla el gobierno con los que habla los responsables de los ayuntamientos me puede hacer así y yo le puedo hacer así señor otero porque es que esto es así es su palabra contra la mía

y entonces yo le digo no perdone es que no es verdad es que no es verdad ni que ura ni que el gobierno no hable con los entes gestores

le he puesto el ejemplo de busturialdea porque este fue un tema muy sensible en este parlamento entiendo que es uno de esos entes

habla más que con otros y usted sabe cómo llegamos al tema de busturialdea y lo complicado que fue y cuál fue el presupuesto primero que se encontró el señor arriola cuando fue elegido consejero

en todo lo que tiene que ver con las políticas de agua por lo tanto no creo que sea el mejor ejemplo para traer hoy aquí cuando venimos a hablar de un canon que como le digo usted ha dicho que sí pero no bueno pero tal pero a la hora de la verdad cuando estamos debatiendo

el gobierno tiene una labor que es traerlo y debatirlo y no lo deja para el último día porque usted sabe como un parlamentario con experiencia que el proyecto presupuestario no se trabaja en octubre se trae en octubre y se debate en diciembre es un procedimiento que viene de largo

por lo tanto esto no es así y usted lo sabe perfectamente igual que yo pero aquí hay una posición

tiene presentar enmiendas o no si trae enmiendas sostiene su discurso a través de todo aquello que presenta si no trae enmiendas hombre pues en fin lecciones en esto pues creo que no es justo y así como tengo que decirle al partido popular que no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho

ha intentado utilizar la herramienta parlamentaria para poder modificar aquello con lo que no está de acuerdo pero no se puede estar de acuerdo

pero a la hora de modificar para darle la razón a aquellos entes gestores que usted dice que ha hablado con ellos para eso no lo hago porque esto no es coherente queremos proteger el agua como recurso escaso sí o no hay que hacer lo que tenemos que hacer o vamos a escuchar solo una parte

la opinión es diferente si hablamos con los consumidores y si hablamos con los ayuntamientos que son aquellos que son responsables de todo lo que tiene que ver con el saneamiento creo que debiéramos de mantenernos en una posición coherente y sobre todo respaldada de actividad parlamentaria que es lo que nos compete a todos y cada uno de nosotros en esta cámara nada más muchas gracias

en busturialdea si se iba a respetar el convenio que se había firmado en dos mil catorce dos mil quince que terminaba en dos mil veinte

ura etcétera la respuesta del señor arriola fue por falta de disponibilidad presupuestaria no se va a poder hacer vale

yo le digo de lo que me acaba de contestar el señor arriola nosotros lo que les estamos diciendo es que estamos somos favorables al canon de agua y somos favorables a que

lo que les estamos diciendo es que ustedes van a crear un fenomenal problema de equilibrio territorial insisto una vez más

de tuberías el consorcio de aguas de busturialdea da agua a cuarenta y cinco mil personas con ochocientos cincuenta kilómetros de tuberías ura va a destinar todo ese dinero a dónde a quién en base a qué estudio

fue por unanimidad que para el octubre de dos mil dieciocho iba a haber un plan integral para la mejora de las masas de agua en la que se iban a hacer los estudios económicos en las que se iba a haber cuál eran las necesidades tenemos ese estudio no tenemos fue acordado por todos sí el límite era hace más de un año y dos meses y no se ha presentado así que ahora no me digan que cuando intentan meter esto dentro de la ley de presupuestos

y haciendo como los estudiantes que no han hecho sus deberes que estaban acordados por todos y venir ahora con estas eta amaitzen dut becerra jauna

y aquí es evidente que aquí a por lo que va ura y es una intención declarada desde hace tiempo es a cargarse

centralizada la idea es ahogarlos económicamente

un problema financiero inversor a todos aquellos consorcios que no son aquellos con los que ha hablado el gobierno que no sé si son los que lógicamente

como añarbe o como bilbao bizkaia no los consorcios grandes

y si podemos decide que esta ley tiene que pasar

haciendo los informes económicos etcétera etcétera ustedes todavía están a tiempo

de que están ustedes a tiempo de votar a favor de esta iniciativa que va a llevar esto por un cauce mucho más democrático vamos a decir mucho más transparente

porque hay un montón de gestores entre otras entidades que no han sido escuchados y ustedes si no votan a favor de esto

esta ley este cambio de ley se apruebe sin que sean escuchados eso no es entiendo el modelo de gobernanza que debe impulsar podemos eskerrik asko otero jauna

bai bi ideia botatzea bakarrik empiezo por orden señora lópez de ocariz principios rectores de la ley de agua habla de la cantidad utilizada y de agua consumida ahora le hago yo la pregunta el agua que se consume cuál es la que sale del grifo

pues el río le dirá que la que se capta segunda

al señor otero el presupuesto modifica el régimen tributario es algo que tiene sentido no es que

que la ley de segunda oportunidad cambiaba asuntos relacionados con seguros de salud o con la ley del juego o que

tiene sentido que el cambio tributario se haga mediante una disposición en los presupuestos

de la inversión no la va a arreglar una aplicación asimétrica del canon del agua y el mejor ejemplo lo ha dicho usted busturialdea

de que la reordenación de la inversión se tiene que hacer desde más arriba

y después desde arriba el gobierno invierte en aquellas zonas que tienen más necesidad y precisamente me lo ha puesto usted fácil porque busturialdea es el ejemplo en euskadi
sus inversiones en saneamiento son el ejemplo de euskadi de ello eskerrik asko eskerrik asko

y lo que han movido sus planes es cero milímetros y después si quiere hablamos de esto beste kontu bat garrantzitsua

de veintisiete millónes de euros para las arcas públicas vascas orduan errentagarria nik galdetu nuen

si está explotando de manera rentable pozos por qué se le tiene que seguir dando dinero y entonces la señora tapia

laugarren putzu bat laugarrena viura primero viura tres viura primero y el que están tramitando ahora

o sea van por cuatro pozos en un yacimiento supuestamente convencional y supuestamente rentable

que necesita dos coma cinco millónes de euros del eve y va a ser que en el ejercicio va a perder más de cuatro millónes de euros pero qué rentabilidad es esta de qué estamos

el que falta van a ser diez todos el cien por ciento han resultado en un fracaso en solo dos ha actuado como operador

porque si de lo que se trata era de conseguir el recurso autóctono pues el de la rioja yo no creo que lo consideremos

utilizando una técnica de palo y zanahoria para seguir buscando la manera

que nunca devuelve a la administración en modo de rendimientos y yo creo que para entender esto y lo voy a hacer muy brevemente es muy interesante ver lo que pasa en gasteiz allí donde se iba a hacer fracking allí en

y allí donde se ha aprobado recientemente la declaración de impacto ambiental para hacer

en el noventa y siete en el noventa y siete hidrocarburos euskadi perfora el armentia primero el resultado el resultado como dijo

fue un fracaso fue la producción fue ridícula cero coma cinco

entonces en el dos mil tres eso se cierra el dos mil cuatro

socios americanos ya pidiendo una serie de permisos vale que se les concede en el dos mil seis dos años después

manda manda peticiones para hacer dieciséis pozos en diferentes sitios

si usted va a hacer esto usted necesita hacer un informe de impacto ambiental porque esto va a tener una afección ambiental y entonces

una trampita legal trampita y dice no retiro quince me quedo solamente con el pozo de vitoria con el pozo de gasteiz y solamente va a ser ese

voy pidiendo de uno en uno todos los pozos para que no tenga que hacer el estudio de impacto ambiental y no me los lleven a declaración de impacto ambiental así es como consiguió

diez pozos en trámite muchos de ellos aprobados pero no solo eso sino que en gasteiz tuvieron otro problema

a que se iba a perforar el que se iba a perforar con fracking en el dos mil diez once doce en ese periodo

tenía una protección valor natural y valor forestal etcétera entonces el ayuntamiento de vitoria dijo esto no lo podéis hacer aquí entonces hidrocarburos de euskadi qué hace dice ah bueno pues me cambio a la parcela de al lado

eso sí pero con los estudios de impacto ambiental ya aprobados y mientras tanto intento seguir peleando que a pesar de que las normas urbanísticas impiden hacer el pozo en ese sitio se haga se haga el pozo se haga el pozo a ellos que se les dé el permiso validándolo

el ayuntamiento no le da el permiso evidentemente luego empieza todo el lío

con la ley y con la decisión del gobierno que no se va a hacer fracking de pronto de pronto después de que hidrocarburos euskadi y su director vicuña la anterior corporación del psoe garmendia etcétera se hubieran paseado por todo euskadi diciendo que eso era una

se podía explotar con una técnica no convencional es decir con el fracking y con estimulación resulta que de pronto se puede se puede hacer

los informes después de que se nos ha dicho por activa y por pasiva que no podía ser es decir o sea ha estado trabajando de una manera yo diría chapucera porque además cuando meten cuando meten el informe para la declaración de impacto ambiental del pozo armentia que es el que tenemos ahora en cuestión resulta que lo meten en el mismo espacio en el que el ayuntamiento de vitoria ya les había dicho que por el plan general no estaba permitido entonces bueno la declaración de impacto ambiental ya la tienen hay algunos detalles más pero el tiempo se me acaba y no voy a no voy a seguir pero está claro

ha actuado de una manera bastante chapucera en resumen el tiempo de hidrocarburos de euskadi ha terminado es incompatible esta búsqueda con la declaración del cambio climático y con el objetivo de neutralidad de carbono a dos mil cincuenta es menos compatible aún con la idea de administración ejemplar

que supone un roto para las cuentas públicas y además ha actuado de manera bastante chapucera durante largos años lo raro no es que pidamos

arazo gehiago sortu gabe desde el principio nuestro grupo desde que está en este parlamento

no es una iniciativa política no es una iniciativa política que se le haya ocurrido al grupo eh bildu

en noviembre de dos mil catorce una plataforma en la que está eh bildu en la que está ezker anitza izquierda unida y en la que también está

desde el principio por lo tanto cuando el señor mikel otero registra esta petición en

y hasta que lo debatimos ahora han pasado cinco años han pasado cinco años para que este tema llegue al parlamento hoy

en este tiempo ha habido profundos cambios en el panorama energético también en el panorama energético vasco en dos mil catorce como ya ha dicho el señor otero

activamente era el líder del fracking en euskadi no solamente estaba el permiso saila en bizkaia estaban los pozos en araba y burgos

y apenas seis meses después de que se pidiera por parte

en junio de dos mil quince se aprobó en este parlamento la ilp contra el fracking con más de cien mil firmas y con la abstención del partido nacionalista vasco

y con una sentencia del tribunal constitucional por el medio en mayo de dos mil dieciocho es decir seis meses antes de que el señor otero presentara su iniciativa sí se aprobó sí se aprobó en este parlamento una pnl sobre el fracking por unanimidad unanimidad es decir que desde dos mil catorce hasta mayo de dos mil dieciocho ha habido un cambio ha habido un cambio en la forma en la que el gobierno

sobre fracking se produjera también sobre la exploración convencional convencional de gas

profundos cambios en la rentabilidad económica del gas respecto a las energías renovables y aquí les voy a poner un gráfico siento que no se vea mejor donde se ve la evolución de los costes de las diferentes energías a lo largo del tiempo la nuclear es la más cara

y a continuación ahora es la línea verde es el gas qué cambios se han producido en el dos mil diez la energía eólica ya era más barata que el gas en el dos mil quince cuando se aprobó la ilp del fracking la que ya era más barata que el gas era la energía y posiblemente eso tiene que ver mucho también con el cambio en la postura del gobierno en esta materia pero además se han producido cambios sociales profundos

gritando no queméis nuestro planeta y eso se refiere a las energías fósiles por lo tanto hoy el asunto central me va a permitir el señor otero no es tanto la desaparición de shesa sino si somos capaces

no ya dos mil cincuenta sino a ser posible a dos mil cuarenta que haga irrelevante

es una sociedad pública y como todas las sociedades públicas es un mero instrumento

es un instrumento de la política energética es un instrumento caduco y es un instrumento de una política energética que durante muchos años ha sido equivocada y lo mismo que shesa es solo un instrumento también lo es esa nueva sociedad que hemos creado para el desarrollo de la energía eólica a medias con iberdrola pero son meros instrumentos

no cambia la política no cambia la política es meramente simbólico

por eso cuando hace ya un año para que no se nos ocurra pensar que nuestra enmienda tiene tintes presupuestarios

enmendamos la proposición no de ley del grupo eh bildu lo que pretendimos fue

evitar los problemas que una desaparición de una sociedad pública de ese tipo podría tener tanto para el personal que trabaja allí como para los activos

en pozos ya en explotación como permisos de investigación que podrían pasar a manos privadas y por eso en nuestra enmienda

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señoras consejeras señorías buenos días a todos a mí esto de la sociedad de hidrocarburos de euskadi el nombre como tal

como a viejuno a casposilllo a antiguo me recuerda a estas empresas

a estas empresas de antes de la democracia que teníamos más propio de regímenes totalitarios donde la administración tenía que incidir

la actividad empresarial privada a través de instrumentos como este que se mantienen otros países aquí pues ya prácticamente no pero en otros países se mantiene especialmente en los países totalitarios

ese tipo de empresas que lo que explotan son desde el punto de vista político intereses muy muy particulares y la riqueza del país la dirigen unos pocos que son los que copan el poder y no precisamente por métodos democráticos pero

de la empresa y lógicamente no somos tan frívolos en el partido popular para

entonces lo que a nosotros nos lleva

nos lleva partiendo de posiciones de lo que es la economía la política y la visión de la administración y cómo debe funcionar la administración tan dispares como la que tiene el partido popular el grupo popular en este caso eh bildu y elkarrekin podemos a la misma conclusión y es que yo

por qué porque nosotros entendemos que hay que dejar al tráfico entre las empresas y las empresas privadas hay que dejarles que ellos

cuestionamientos y planteamientos y ámbitos muy concretos sí es necesario la presencia de las administraciones públicas dirigiendo

por defender determinados recursos

sea necesaria la presencia de empresas públicas y la presencia de las administraciones pero en el caso concreto en el objeto social de shesa esto de la prospección la investigación la extracción el transporte la venta la distribución todo hasta refinado todo eso yo creo que es algo que está perfectamente regulado que la legislación es muy

y ya hay empresas privadas caray que si las hay que se dedican a hacer eso y que lo hacen

multinacionales incluso muchas de nuestro mismo país que se dedican a hacer ese tipo de actividad dentro y fuera del país pero es que además lo curioso y aquí está el señor otero cuando hacía la presentación nos hablaba de los pozos de

qué sentido tiene que una empresa vasca de propiedad

se dedique a hacer esta explotación mercantil fuera del país vasco yo sinceramente no le veo mucho sentido creo que más de uno levantaría la mano y pegaría un buen berrido si de repente aquí nos encontramos con que a explotar

ya no quiero contar si es de castilla león y o si es andaluza o canaria pues alguien diría pero qué están haciendo estos que vienen aquí y este gas es nuestro y golpes en el pecho y este tipo de cosas que se suelen hacer

porque además estamos practicando realmente una competencia a esas empresas privadas pues que no es muy leal porque las cuantiosas pérdidas a las que el señor otero ha hecho referencia caray se van cubriendo con el dinero del erario público

pagan sus impuestos importantes impuestos los que pagan muy importantes impuestos los que esas empresas pagan y con ese dinero que nos pagan

y vamos cubriendo las pérdidas que esta empresa pública tiene yo de verdad no le veo sentido ni desde el punto de vista de la sostenibilidad que no voy a entrar porque yo no soy el experto y creo que lo han definido muy bien las dos personas que han intervenido

de explotación mercantil desde la administración pública desde el punto de vista de la competencia tampoco le veo mucho sentido y entonces uno se pregunta y por qué existen todas estas empresas no sé por qué

la ley nos permite que este tipo de empresas públicas existan y ya le he dicho que en ocasiones estas empresas existen precisamente para proteger o bien sean los intereses del ciudadano o bien sea una materia prima concreta o bien sea una actividad mercantil

intereses estratégicos de la administración pública de los países bien

uno se para a pensar y dice caray entonces para qué existe si eso no es el caso para qué existe históricamente para qué se han creado todas estas empresas públicas muy sencillo sencillísimo

un poco más igual estas empresas siempre se han creado

la legislación de contratos del estado contratos de las administraciones públicas ha evolucionado pero siempre en el mismo sentido cada vez ha ido controlando más y constriñendo más la actividad de los contratos de la administración pública para qué para que en un único sentido eh no ha habido variaciones en cuarenta años no no no en un único sentido para qué para que realmente lo que se beneficie sea

no el interés de quien dirige la administración y no el interés de la persona que es contratada por la administración claro como esa situación se iba complicando a lo largo de los años y de los años y de los años alguien dijo eureka tenemos que cambiarlo y qué hacemos vamos a crear sociedades públicas vamos a crear sociedades públicas que desde las sociedades públicas

y es mucho más fácil hacer determinadas contrataciones que desde la propia administración pública no podríamos hacer pensando en quienes deben ser los beneficiarios y luego hay otra fórmula el

txiringuitos vamos a crear empresas públicas para colocar a la gente

pero bueno la gente también puede entrar en la administración pública y dice sí pero claro principios de igualdad mérito capacidad hay que pasar los exámenes hay que estar preparado hay que ser mejor que los nosotros y uno entra pero si no estamos en esa situación dice pues bueno pues una empresa pública oye voy y te coloco y eso es sencillísimo de hacer y lo hemos visto a lo largo de la historia

donde una empresa de estas de selección de personal y se le dice hazme una selección de personal para contratar a este señor y dice no a un señor como este y dice no no no a ese hacemos la selección de personal cogemos y lo contratamos y ahí lo tenemos puesto

esas serán las mañas para las que se utilizaban las empresas públicas y yo creo que ese tiempo en un gobierno

pues no deben pintar nada empresas públicas como esta y por eso nosotros estamos a favor de que efectivamente se estudie la forma en la que

para dejar que esa actividad que no es buena para nuestros objetivos medioambientales continúe para dejar de perder dinero y ese dinero que ya sabemos que bueno sí pues hablaba el señor otero de ciento cincuenta millónes de euros un montón de años

pues no es dinero pero vendría bien para otras cuestiones estoy seguro que sí se le ocurrirán montones de usos para darle a esas cantidades y sobre todo para vamos a hacer

esa sombra que hay en todas las empresas públicas

y esta semana hemos tenido o hemos sentido yo creo que todos náuseas bastante de ese tipo de contrataciones raras que se hacen desde las administraciones públicas y no es el objeto del día por eso no voy a entrar que bastante se nos ha revuelto el estómago para como

minutos del aperitivo de navidad por eso nosotros estamos a favor de la desaparición de esta empresa gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

a todos yo voy a ser muy breve porque la iniciativa que planteaba hoy el señor otero era sí o no al mantenimiento

el grupo parlamentario socialista va a votar que permanezca donde está permanezca donde está no por falta de coherencia y se lo voy a explicar y

con el grupo socialista en multitud de ocasiones en lo que tiene que ver con la política energética

en el que no estamos de acuerdo en el cien por ciento lógicamente somos dos partidos políticos diferentes con dos ideologías diferentes pero tenemos firmado un acuerdo de gobierno para darle estabilidad al país y para poner en marcha políticas que puedan solucionar la vida de los ciudadanos

y por tanto la política energética que nosotros refrendamos y en la que nos sentimos

es la que hoy defiende teresa rivera y en el anteproyecto de ley que habla de cambio climático y de transición energética que esperemos sea una de las primeras leyes que apruebe el futuro gobierno por tanto no me voy a esconder en hablar de en intentar justificarle lo injustificable porque ya sé lo que usted me diría porque se lo iba a poner

para que no quede ninguna duda porque ya somos viejos conocidos

como el señor iñigo leza con quien debatí durante más de seis años todo lo que tenía que ver con la ley del fracking

igual que estamos en contra de que se modifique un plan general de ordenación urbana en un ayuntamiento para hacer posible algo en lo que no creemos

por las energías renovables pero también creo que hay que tener cuidado en ese debate de gastar dinero porque a veces hay que hablar de inversión la energía renovable cuesta mucho dinero

durante los primeros años de inversión en los presupuestos nos daría números rojos pero es algo por lo que hay que apostar a donde tenemos que tender porque desde luego el grupo socialista

de un presente sostenible y de un futuro sostenible desde luego creo que se están haciendo muchas cosas por parte del gobierno vasco el fracking ya no es una realidad ni se pone

el tema que usted ha traído a debate aunque no hablaba de eso realmente la iniciativa

es gas convencional comparto con usted que no es tan rentable o no parece ser tan rentable como parece pero también es verdad que un gobierno responsable tiene que intentar ser capaz de dar respuestas a una demanda en una sociedad como la vasca que tiene el nivel de dependencia que supera el noventa y cinco por ciento dicho sea esto

muy cómodo y está donde quiere estar gobernando con el partido nacionalista vasco porque son muchas más cosas las que ponemos

quien lo pueda leer hay un párrafo taxativo que habla de lo que tiene que ver con política energética en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo y es eso lo que defendemos

es teresa rivera nuestro referente en política energética ella y todos los documentos que el ministerio

proyecto de gobierno si es posible que pedro sánchez gracias a la responsabilidad de todos sea presidente lo antes posible

de poco sirve y por tanto quiero que quede claro que estamos en un gobierno de coalición y que efectivamente

del gobierno y desde luego no será el partido socialista quien vote para que salga y lo último que le voy a decir al señor arbulo es en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho fueron dos años en el que el partido popular

y por lo tanto se le dio el visto bueno a que shesa formara parte de la estructura del gobierno entiendo también que será

dejando cosas en la gatera como hacemos todos cuando intentamos pactar y consensuar entre diferentes pero eso no ocurrió hace treinta años porque luego ha habido una prórroga presupuestaria en la que sigue dando el visto bueno a shesa

por lo tanto yo entiendo que ahora lo tengan todo ustedes tan claro pero no lo han tenido siempre tan claro porque también aquí aprobaron en euskadi fracking no y su gobierno nos llevó

por lo tanto pactar entre diferentes es muy complicado la política energética es más que complicado y a los hechos me remito porque no somos capaces de sostener un debate claro por mucho que hagamos pactos de país leyes de sostenibilidad acabamos poniendo todo en cuestión porque esto es mucho más complicado de lo que parece

las empresas están fuera y tiene una parte fundamental en lo que tiene que ver con poner en marcha proyectos que hagan crecer al país porque la energía es verdad que las leyes las marca el parlamento vasco con nuestra aprobación o no pero como digo luego

mire dónde estamos que no hemos sido capaces de pactar nada en lo que tiene que ver con las energías renovables digo nada nada real o sea no nada que sostenga el papel y la tribuna

porque luego parece que unas cosas décimos otras cosas negociamos y cuando llega la hora de votar muchas veces otras cosas votamos

no sé si alguien en esta cámara tiene el portal de su casa bien barrido

todos por lo tanto pretendo no intervenir en el segundo turno depende señor otero de lo que usted me diga por tanto les deseo felices fiestas aunque
no me gusta nada la navidad pero para los que les guste disfruten eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak

kontu honetan euzko alderdi jeltzalearen joera zein den probablemente como decía el señor becerra

es si estamos de acuerdo con que se extraiga el gas o no y para eso no hace falta venir una vez al año o dos veces al año una vez si porque una empresa pública que no tiene rendimientos qué tela

el desempeño de la empresa pública no nos gusta otro año es porque la evaluación de impacto ambiental es simplificada y debe ser normal cuando es normal tampoco vale pues bueno pues al final

se puede resumir en uno no queremos extraer en este caso en suelo alavés ese es el final del y el principio del argumento del señor otero que hoy ha disfrazado de digamos de rigor

creo que ninguno de los que han intervenido salvo quizás el señor ruiz de arbulo plantear realmente si cerrásemos

la proposición no de ley que nos ha presentado euskal herria bildu qué pasaría después

la que estudia la que investiga la que mira es medioambientalmente malo pero

que son los que entrarían exactamente al día siguiente una vez de hacerse cargo de unos activos mal vendidos seguramente señor becerra

que lo hacen o que lo harían mucho mejor yo no sé a santo de qué

a estas conclusiones y otra cuestión

tan o más importante yo no sé si aquí en nombre del ecologismo

es en el que mañana dejamos de utilizar el carbón el petróleo el gas y vivimos única y exclusivamente de las energías renovables pero yo creo que ustedes saben también como yo que eso no se va a dar de un día para otro que va a ser un proceso

y que en ese proceso mientras subimos en el uso de energías renovables y aquí tenemos un largo recorrido

el carbón el petróleo bajarán y qué va a pasar con el gas va a bajar también su uso no

se va a utilizar más y por lo visto por lo visto según su teoría

que da de obtener el gas aquí mismo y ponerlo en circulación por lo visto debe ser mucho mayor que traer todo ese gas en barcos

un gas que una vez aquí otra vez hay que someterle a un proceso de licuefacción utilizando energía gastando más energía y demás pues por lo visto eso debe ser

amén de como digo de que la ciudadanía vasca perdería en este momento algo que es suyo algo con lo que podemos ir con lo que podemos venir que podemos utilizar o dejar de utilizar pasaría a manos privadas

a lo que ellos aspiran aquí porque en bueno quizás sea

en juntas generales de álava mejor dicho no hace ni un año que defendían algún otro tipo de planteamiento

porque parece lógico incluso parece bueno que seamos nosotros quienes tengamos

y no las empresas privadas a las que habría que como digo malvender los activos de la compañía en el caso de que el gobierno vasco constituido en consejo de administración tomase la decisión

de liquidar la empresa a mí sí me gustaría que hablásemos de ese día después de esa transición ecológica

muchas veces de acuerdo con teresa rivero también cuando da el permiso al gobierno vasco para que explore

en esa cuestión y más adelante pues ya iremos viendo quiero decir que esto no es blanco las cosas tienen muchos vértices tienen muchos ángulos tienen muchas

expectantes a ver qué sale de esa comisión en la que hemos de alguna manera delegado el diseño del futuro

de que algunos confunden transición energética transición implica

todo ese camino que hay que recorrer en el tiempo con

pasar de un día para otro de una cosa otra esto no lo vamos a conseguir ni aquí ni en esa alemania

de ejemplo por lo tanto yo pediría tranquilidad vamos a ir viendo qué pasa con esa ley que nos anunciaban del posible futuro gobierno de españa vamos a ver qué dicen nuestros expertos y a partir de ahí ya tomaremos ya tomaremos las decisiones que tomar

siempre nosotros sí queremos saber qué hay en nuestro subsuelo y a partir de ahí las decisiones sobre la explotación se tomarán en cada momento y siempre garantizando

que esa explotación se hace con todas las garantías para el medio ambiente y siempre intentando que la huella ecológica sea la mínima posible cosa que creo no sucedería o no sucede a día de hoy y no sucederá mañana si seguimos trayendo

de acuerdo con que se extraiga el gas o no es verdad ese debate ese debate existe y a cerca de los ritmos que tiene que tener la transición y desde luego euskal herria bildu no está diciendo que tenemos que cortar el gas de un día para otro porque armaríamos un caos importante

estratégicos para los que fue creada y que sigue siendo un coladero de dinero público y que hidrocarburos de euskadi lo único que busca es autoperpetuarse

para mostrar o demostrar a qué se dedica cómo lo hace y no está teniendo éxito no está teniendo éxito dentro de las fronteras de araba bizkaia y gipuzkoa no está teniendo cuando ha salido fuera y no está teniendo éxito cuando se ha ido en join venture con unión fenosa y compañía y nos intenta convencer de que sí está teniendo éxito cuando no está teniendo éxito si se cerrara qué pasaría al día siguiente pues lo que pasaría al día siguiente sería nada que

porque lo que ha pasado con el resto de empresas extranjeras que habían venido a la cuenca vasco cantábrica es que de la misma manera que habían venido se han pirado se han pirado r dos compañía todos aquellos que estaban en el lobby shale gas españa y junto con hidrocarburos euskadi que estaba poniendo dinero público para hacer en el estado español que tiene tela el asunto año dos mil doce dos mil trece todas esas compañías se han ido yendo por qué porque

de tractora de otras empresas extranjeras para ver si picaban digamos en el anzuelo en el negocio del fracking intentando poner la alfombra roja el tiempo ha demostrado que eso no tenía ni pies

en los yacimientos no convenciones que hay mayoritariamente en la cuenca vasco cantábrica no tienen el potencial suficiente como para seguir en ello pero hidrocarburos euskadi como no tiene que dar cuentas

consejo de administración privado lo que hace es seguir pidiendo dinero

va a ser de un agujero que son los agujeros que hace

un agujero de veintisiete millónes de euros a las cuentas públicas vascas que es normal que haya ahí seis personas que están trabajando que lo que van a hacer es seguir presentando proyectos y seguir pidiendo dinero para que se les siga suministrando pero no tiene sentido en este momento mucho menos cuando la administración tiene que ser ejemplar evidentemente que se trae parte del gas en barcos y se va a seguir trayendo porque desde luego con la producción que tiene hidrocarburos euskadi no vamos a ningún lado y mucho menos con la que tiene

y gipuzkoa con respecto a las empresas privadas solo un apunte señor ruiz

no es que esas empresas privadas fueran a venir por placer o por gusto sino porque

hacía de enlace ante las resistencias que pudiera haber para que vinieran si hidrocarburos de euskadi desaparece las empresas extranjeras como han desaparecido en el resto de permisos van a desaparecer con respecto a lo que ha dicho la señora rojo

sincero que ha pasado aquí en estos últimos tres años vale

lealtad institucional ustedes están cómodos gobernando ustedes sabrán por qué

que hay que votar y bueno eso es ya sería otro problema pero por lo menos le agradezco

y para marear la perdiz señor becerra su intervención porque no me ha quedado nada claro si de lo que se trataba era de darme una demostración de que antes de que yo existiera en el mundo de la energía había más gente que seguro que sí no necesito ninguna exclusiva usted me ha dicho que equo estaba en gure energia y que gure energia en el año dos mil catorce estaba pidiendo la desaparición de shesa

ah porque usted vota a la suya y por qué hoy a la mañana hemos acordado en el ayuntamiento de vitoria una enmienda transaccional y usted no ha querido acordar conmigo ninguna enmienda transaccional ah porque a usted o sea le gusta lo que nosotros proponemos

hacer transaccionales con nosotros pero usted hoy no

cosas de la vida presupuestaria señor becerra cosas de la vida presupuestaria claro yo le dije la teoría de las tazas de mierda es un poco soez no la voy a repetir pero desde luego hoy no es una taza esto es casi casi una palangana

bueno hoy ese es el debate porque lo hemos traído nosotros y lo hemos traído en estos términos usted dice que no que la idea es lo importante es el pacto carbono cero etcétera eso también lo hemos traído

me las dejo en el tintero porque también han venido y claro que el asunto es importante

desaparezca que se lleva dos millónes y medio de euros del presupuesto del ente vasco de la energía un año más
un año más cuando se supone que está explotando un yacimiento amaitu mesedez

amaitzen dut y desde luego en contraste un poco también con lo que ha dicho la señora rojo por favor

sea un poco más sincero sean un poco más sincero desde elkarrekin podemos

lo que no vale lo que no vale es hacer el lavado verde ustedes precisamente y mandar a los periodistas a hacer este titular

de la exploración de gas en varios permisos y después dicen dentro

muy bien y voy a las enmiendas y me encuentro con que meten una enmienda que pide bajar setecientos treinta y tres mil euros el presupuesto de hidrocarburos de euskadi y luego hay dos una de cuatrocientos mil y una de trescientos treinta y tres mil

y después van vendiendo en la prensa que les están bajando el presupuestado a hidrocarburos de euskadi

porque no solamente la señor rojo ha sido sincera sino que por fin

venimos a lo que es esto usted no tiene ningún interés

usted ahora está intentando convertir a elkarrekin podemos en el culpable de la política energética bueno

aquí que ya lo ha explicado y lo tendrá que explicar fuera en el primer punto de nuestra enmienda dice el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que declare

empiezo como acabamos hace dos semanas qué no ha entendido de nuestra enmienda qué no ha entendido de nuestra enmienda lo único que hacemos es matizarla porque si se declara la extinción qué pasa con los trabajadores y qué pasa con los activos que ya se ha dicho aquí el pozo armentia dos por ejemplo

el treinta y seis por ciento es de petrichor filial de ico con sede en texas y pensilvania y el veinte por ciento es de cambria

entonces qué pasa si se va shesa del pozo armentia dos que es ahora mismo la única exploración que ahora mismo está en marcha usted dice se cae y yo digo yo no lo sé si se cae o no

aquí el problema lo he dicho desde el principio es que shesa es un mero

equivocada del gobierno y por lo tanto aprobemos lo que aprobemos hoy no deja de ser simbólico por mucho que usted lo revista de una trascendencia que no tiene es simbólico

elimina como quiere el problema si no cambia la política energética nos da lo mismo es más

preferimos que lo hagan empresas privadas si se lo está diciendo por qué cree que el pp le va a votar a favor porque cree que le va a votar a favor

y aquí tenemos un pacto vasco de la energía que por cierto nosotros nos abstuvimos que debería de ser el marco

debería de serlo deberíamos ponernos a ello y eso se lo lanzo también a los del gobierno porque el señor el señor grajales cuando empezamos

yo creo que ahora ya nadie habla más de dos mil cincuenta y con las cifras económicas que le he dicho ahora mismo investigar en el gas

para un recurso que no se va a poder utilizar porque es antieconómico utilizarlo pero como he dicho

varias semanas tirándome de la lengua debería plantearse por qué

entre el gobierno y elkarrekin podemos hay pacto y por qué aquí habiendo el mismo acuerdo presupuestario no puede haber pacto pregúntele

por qué aquí ya no podemos pactar haciendo como hacen ustedes que elkarrekin podemos sea digamos el toro que mató a manolete se lo dije la vez anterior los setecientos treinta y tres mil euros de reducción de shesa son tal

de reducción usted sabe que las partidas de ajuste presupuestario

un abandono progresivo de la investigación en gas natural en algunos yacimientos lo ha firmado el gobierno ahora si usted presentó

en octubre de dos mil dieciocho me pregunto por qué el año pasado no la defendió según la presentó puede ser que entonces estaban negociando ustedes presupuestos puede que sí

negociaron cero y acordaron cero y firmaron cero por supuesto

ni nada más a ustedes les parece poco lo que hemos conseguido y yo lo admito pero es que ustedes consiguen nada eskerrik asko

en estos debates se aprende mucho la verdad que cuestiones tan técnicas son muy interesante y uno aprende porque

raro ahora que traten de convencerme de que el subsuelo de euskadi llega hasta la rioja en fin me parece que eso es

de engañar la relación entre

la misma enmienda los dos grupos no hay manera el mismo texto piden lo mismo

de llegar a un acuerdo algo será algo está pasando con estos pactos y estos matrimonios recientes que ha conseguido usted que se revuelva mucho la oposición yo he dicho que estoy a favor que mi grupo está a favor de que efectivamente esta empresa desaparezca

y no sé por qué el señor grajales confía tan poco en el gobierno que dice que si desaparece shesa se malvenderán sus activos no señor sus activos y sus pasivos pasarán al gobierno que es el propietario de las participaciones eso es lo normal ya nos comemos bastantes marrones cuando una cosa de estas no funciona y nos tenemos que tragar las deudas bueno pues si hay activos que valen dinero no hay por qué venderlos

yo digo que este instrumento no me gusta y lo que tampoco me gusta es qué es lo que está pasando entre elkarrekin podemos y eh bildu yo le voy a solicitar señor becerra que por favor me permita votar por puntos

su enmienda la enmienda que ha realizado me dice que no pues si me dice que no a mí usted me recuerda al chiste este del cazador que iba a la cueva a la madriguera del oso y al cuarto o quinto sábado después de veinte mil

pues creo que aquí pasa exactamente lo mismo señor becerra porque usted tiene aquí

que el señor otero oye le pedimos que votemos todos por puntos se lo apoyamos le sacamos su iniciativa y usted no quiere por qué

no tiene sentido no tiene sentido yo creo que si estos matrimonios y estos cuernos que ha habido últimamente que están ustedes muy enfadados

de sesiones que volvemos a traer este tema con más tiempo con más sosiego

podremos debatirlo yo le voy a insistir le pido que por favor nos permita votar por puntos porque entre otras cosas la segunda parte de su enmienda señor becerra claro es una enmienda antigua es cierto que

no tiene ningún sentido los activos en las condiciones en las que está y que ha pasado

la virtualidad que tienen las pnl pero hombre vamos a hacer una un poco más seria y como se ha quedado un poquito vieja la suya yo le pido déjeme que bote por puntos

y entonces sacaríamos adelante este debate sí es que el interés del debate

y si no es el interés es echarse en cara los unos a los otros

con tranquilidad y ya está y nos olvidamos de este asunto insisto y reitero la